isiliarekin enrique casas eta fernando buesaren homenez

geratu me sigue sin funcionar no está nada activo ahora espera cuando activemos a ver ni siquiera el amarillo todos tenemos encendido no cuando activemos vamos a ver qué pasa aldez aurreko bigarren gaia aldez aurreko gaia behin betiko ebaztea otsailaren hamaseiko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

está bien metido no sí vale bozkatu dezagun

y recurrido en otra dando como consecuencia un autogobierno flotante

en la medida que no pueda hacer frente a los retos de su sociedad

andrea legebiltzarkideok el pasado enero

un debate para aprobar la constitución de una ponencia específica sobre autogobierno que señalaba claramente la voluntad de este parlamento de acordar las bases para un nuevo estatuto unas bases un nuevo estatus

y plural mayoría de vascos y vascas en ese sentido era clara la vocación de este parlamento de abordar lo relativo a las cuestiones sobre el marco jurídico político

pero más aún también afirmaba que estas cuestiones deberán tener como guía fundamental la voluntad política democráticamente expresada de la ciudadanía vasca no solo eso

se incorporaba también un elemento clave la concepción del autogobierno en un sentido amplio que va más allá

que contempla entre otros aspectos la consolidación y extensión de los derechos sociales económicos y culturales la solidaridad intergeneracional el diseño de la arquitectura institucional interna de euskadi o nuevas formas de relación entre las instituciones y la ciudadanía

citas literales de este acuerdo por qué porque

cabemos todas las fuerzas que hay en esta cámara porque en ese marco caben también todas las cuestiones posibles y porque en ese marco también cabe el debate de contenidos que trae la proposición de euskal herria bildu hoy aquí respecto a la cuestión que propone euskal herria bildu de exigir el cumplimiento íntegro del actual estatuto de gernika

especialmente y con el gobierno de rajoy estamos de acuerdo sin ningún problema de hecho ya ha habido sucesivos acuerdos en esta cámara sobre esta cuestión como por ejemplo en el año mil novecientos noventa y cuatro o en el dos mil tres es evidente que existe un serio problema sobre el cumplimiento del estatuto

y de hecho es muy difícil definir cuáles son las responsabilidades sobre esta cuestión

interpretaciones reinterpretaciones protagonizadas por todas las fuerzas que sustentaban el estatuto desnaturalizando en muchos casos el mismo acuerdo

o con leyes de bases abusivas pero también hemos visto cómo

es por ello que hoy hemos traído aquí una transacción que hemos acordado con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista de euskadi que marca

y necesarios uno es continuar con el camino abierto con la constitución de la ponencia de autogobierno y el segundo es exigir sin ambages

del camino que vaya a recorrer esta ponencia de autogobierno se trata de dos vías que perfectamente pueden funcionar en paralelo y que no tienen porqué chocar entre sí el primero

solicitando a esta cámara que se reafirme en los valores acordados hace un mes y poniéndole ya además

definir qué nueva información y que nueva documentación va a necesitar esta ponencia para el desarrollo posterior de sus trabajos el segundo objetivo es igual de claro solicitar al margen de lo que concluya el debate sobre la actualización de autogobierno un compromiso público al gobierno central

y la transferencia de las competencias pendientes a las instituciones vascas

el autogobierno es la mejor herramienta de la que disponemos para blindar y garantizar los derechos sociales de la ciudadanía

la precarización del trabajo es cada vez mayor los jóvenes

o peor nosotros sufrimos una crisis migratoria de nuestros jóvenes estas personas buscan oportunidades fuera es necesario no solo que dispongamos de todas las herramientas que nos corresponden para el desarrollo social de nuestro país

y con audacia que las entendamos como un bien colectivo que permita avanzar en un país menos desigual lo cual a su vez significa tener un país más democrático

y las herramientas que garanticen el aumento de la capacidad de decidir de nuestra ciudadanía para el diseño de un país avanzado democráticamente que puede definir su encaje territorial pero también su modelo económico y también su modelo social unas de esas herramientas

y por ello exigimos de aquí y sin ambages al gobierno central un compromiso público para la transferencia de estas competencias y también pedimos

en los espacios y mecanismos que necesarios para la materialización de esta solicitud de la manera más rápida y efectiva las otras herramientas las tenemos que crear las tenemos que desarrollar entre todas en el marco de una ponencia que nos va a permitir definir un nuevo pacto social entre vascos y vascas que queremos para el desarrollo de nuestro país en las próximas décadas una ponencia en la que tendremos que decidir si queremos un país más democrático más social más participativo

en el que las mujeres estén en igualdad con los hombres o sí por ende queremos un país que es un reflejo de lo que pudo ser nuestra apuesta es clara apostamos por el espacio de la ponencia

a ser referente en políticas sociales innovadoras y blindar muchas de nuestras conquistas

apostamos por el espacio de la ponencia para reconocer la sobresaliente pluralidad identitaria y política propia de la sociedad vasca el reconocimiento de euskadi como nación

me repito cuente con la adhesión de una amplia mayoría social y además de una mayoría transversal en lo identitario y apostamos por el espacio de la ponencia para materializar los cauces legales necesarios para que todo proyecto político pueda llevarse a cabo

eso sí para llegar a este punto no nos hacían falta tantas alforjas y en nuestra opinión no hacía falta llegar a esta proposición porque a ello

esta moción por varios motivos porque su enunciado habla de superar la mala gestión de los límites del actual marco jurídico político

en lo que bildu propone a este parlamento y que este parlamento se pronuncie

sobre la gestión de los límites del actual marco jurídico de lo que habla lo que propone es identificar todas las transferencias pendientes que ya están reconocidas en el actual marco jurídico

luego es verdad que piden identificar otras competencias no contempladas

porque ese grupo también hizo su trabajo en la anterior legislatura esa identificación ya la hemos hecho todos los grupos excepto podemos que las incorporará en los próximos días esas identificaciones están hechas por cada cual con el criterio y visión que cada uno tiene y habíamos quedado de ahí íbamos a hacer el diagnóstico compartido que sentara las bases de un acuerdo habíamos quedado en que no lo hacia el gobierno porque también ustedes desde esa bancada desde bildu han defendido que esa tarea la haga el parlamento no el gobierno y de hecho todos los grupos sin excepción hemos designado ya a quienes queremos que participen en ese trabajo

el debate que todos nos hemos comprometido a trabajar en la ponencia de autogobierno lo único nuevo que encuentro en su propuesta es precisamente esa intención de cumplimentar lo que establece

que conseguimos pactar vascos y vascas de diferentes sensibilidades hace treinta y siete años aunque es verdad que hubo vascos y vascas que no quisieron participar e incluso vascos y vascas que se empeñaron en despreciar y de cuyo desarrollo se inhibieron y por eso destaco esa novedad diré que no de toda la bancada de bildu

de varios partidos y nosotros no tenemos empacho alguno en reconocer que hay algún partido de esa coalición que también ha sido agente activo en la construcción de ese autogobierno

han permitido el mayor progreso que haya tenido jamás este país algunos partidos de esta coalición han estado ahí incluso han sido responsables desde el gobierno

con el nombre que ha elegido en esta ocasión se ha inhibido de ese empeño que otros hemos tenido en construir la euskadi que tenemos una experiencia de éxito se mire

no solo se inhibieron en el estatuto sino también en todo lo demás

en el nacimiento y mantenimiento de nuestra red de protección social en lanbide en la ley de normalización del uso del euskera

sobre la que el otro día oíamos aquí declaraciones de amor en nada de eso ha estado jamás el partido que con sus diferentes siglas representaba una sensibilidad política importante que estaba en este parlamento y quiero quedarme con que ahora sí porque es un dato a tener en cuenta porque ustedes en cada debate también en este sacan a colación el comodín de la soberanía como solución a todos los males da igual que hablemos de las listas de espera de osakidetza que de un conflicto laboral en una empresa

porque los límites del marco jurídico no nos permiten hacer las cosas de otra manera como si la independencia nos librara de circunstancias ajenas a la gestión propia o de obligaciones contraídas con otras instancias superiores

piden un informe de transferencias pendientes que por cierto existe ya en este parlamento y lo hacen intentando poner deberes a un gobierno que lo tenía tan clara como que nació de un acuerdo entre dos partidos que dicen que hay que actualizar ese catálogo

pero prefería no usarlo o usarlo poco o usarlo a veces ya nos pusimos entonces de acuerdo desde otro gobierno de coalición con los mismos partidos que estamos ahora

y que recogía el estatuto y ese informe es una referencia aunque es preciso ponerlo al día porque hay transferencias que ahí estaban pendientes y ahora están asumidas

porque hay otros asuntos incluidas las obligaciones que tenemos contraídos con la unión europea que también requieren de otra interpretación y porque hay cosas en las que diferentes visiones nos han permitido el punto de acuerdo que requiere esa transferencia a los socialistas nos gusta hablar más de materias pendientes que de competencias nominales no por ningún purito partidista es que resulta más práctico es más eficiente

suele generar conflictos ante el constitucional como por ejemplo la ley de vivienda nuestro estatuto atribuye a euskadi la competencia en esta materia la constitución

en cuanto a la regulación de la propiedad privada nosotros estamos convencidos de que esa ley concilia las dos cosas

es nuestra capacidad para reconocer el derecho subjetivo a una vivienda por lo tanto a una ampliación neta de los derechos sociales y para eso no ha hecho falta transferir nada está en vigor y creemos que es

al autogobierno en cualquier caso es indudable que existe un catálogo de servicios que no se han transferido y que exigen negociación sí o sí y esa negociación es bilateral porque ese es el concepto de la comisión mixta de transferencias donde además del reconocimiento lo que se requiere es negociar

tanto materiales como humanos y establecer una evaluación económica porque afecta al cupo por eso décimos que sin perjuicio de empezar a establecer

vamos a actualizar desde el sitio donde estamos todos este parlamento esa ponencia los informes de los años noventa a partir de una propuesta técnica que es así nos haga el gobierno porque los socialistas compartimos esa reflexión de que las decisiones

a partir de interpretaciones solo de parte y la suya muchas veces lo es han impedido completar toda la potencialidad que aún encierra el estatuto tampoco se le pueden poner muchas flores al gobierno de españa en cuanto a la interpretación que hace del autogobierno vasco repetiremos hasta que se nos termine de escuchar que la falta de capacidad política

sobre los jueces donde nunca debiera haber llegado y que ya es hora de sacar esa política de los tribunales y que eso se hace por la obligada vía del diálogo y del acuerdo nos vamos a empeñar en eso y en el pacto que sustenta el gobierno se hace especial hincapié en esa búsqueda sin descanso de cauces para solucionar ese enquistamiento

en si el gobierno de españa está insinuando alguna nueva actitud porque pretende hacer de la necesidad virtud atendemos las cosas que dice aunque está por ver las que hace pero en principio los socialistas apreciamos que se haya abierto un cauce para solventar el problema que lastramos con el cupo que ya no es una cuestión de listado de transferencias sino de lealtad en lo previsto en el autogobierno o cómo se ha evitado que acabe en el constitucional

confirmaba que también se está trabajando para evitar el bloqueo a otra ley muy sentida por nosotros como es la de abusos policiales aunque hemos visto que en otros casos pareciera que no se ha querido evitar en resumen diálogo consenso y legalidad esa es la vía y lo vamos a abordar en la ponencia no es una patada para arriba ante esta moción que sinceramente nos parece absolutamente innecesaria

como voluntad de gobierno si es que todos los grupos están dispuestos a compartir ese análisis sobre lo pendiente

sentencias del constitucional sentencias que son de obligado cumplimiento

pero que incluyen apreciaciones jurídicas discrepantes sobre dónde podemos encontrar también vías para desatascar lo atascado lo digo porque una de las intenciones de esta moción también era reiterar esa especie de demonización permanente del constitucional

la izquierda revolucionaria en una especie de ídolo de masas

que jamás ha apoyado la independencia que puso en marcha la maquinaria de los recortes en cataluña antes que en ningún sitio y que después se abrazó desesperadamente a la causa de la independencia para salvarse políticamente pero bueno citaba las resoluciones jurídicas completas

hay reflexiones muy a tener en cuenta que por cierto han venido de la mano en los últimos tiempos de una persona de la que el señor erkoreka me consta que es fan que es la vicepresidenta de la y tendré que decir que a los socialistas nos enorgullece haber propuesto en su día

que tiene un concepto tan profundo del desarrollo del autogobierno que permite la constitución y de eso nos pondremos a hablar también enseguida y el ámbito lo ha decidido hace un mes

y ahí constataremos de nuevo que esta experiencia de éxito que ha sido el estatuto tiene aún

de que se pueda mejorar desde el consenso y desde la legalidad eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

declarada voluntad de brevedad a ver si soy capaz de hacerlo

brevedad no porque el debate no sea interesante que lo es sino porque

a un debate planteado de nacionalistas para nacionalistas de planteamientos de bildu para medirse con el pnv a ver quién es más nacionalista o quién es capaz de tensar más la situación política en euskadi eso da la sensación escuchándoles a ustedes señora iriarte

para nacionalistas para discutir y ver quién es más nacionalista

pero con todo el respeto les digo que creemos que esto no es ni edificante ni útil ni para euskadi

ni para el conjunto de los vascos desvelaré la incógnita de qué vamos a hacer con su moción señora iriarte anunciándole desde ya que vamos a votar en contra vamos a votar en contra primero porque no compartimos determinados epítetos subjetivos

acusar de mezquino al tribunal constitucional por cierto epíteto subjetivo al que se ha sumado

formas actitudes y manera de expresar voluntades políticas que no se corresponden ni con los tiempos actuales

y desde luego que no aportan nada en positivo y nada edificante y también porque creemos que el texto de la moción dice una cosa pero luego la voluntad del planteamiento del debate es otra

más nacionalismo más independencia y más soberanía y esto no se corresponde con lo que ustedes decían porque es verdad que en su texto señora

de la defensa del estatuto de autonomía algo curioso bienvenidos sean a ese debate

la pena es que no lo han hecho hace mucho más tiempo que nos hubiéramos ahorrado sin duda digo su tradición política o su entorno político

nos hubiéramos ahorrado sin duda mucho enfrentamiento y también sin duda mucho sufrimiento y este debate sobre el pasado que tanto les gusta especialmente al señor egibar que nos viene a hacer habitualmente una demostración de conocimiento de la historia reciente

créanme para nosotros entre otras cosas extraordinariamente aburrido y poco útil poco nos aporta

hacer pedagogía con la izquierda abertzale y ahora se suma a podemos su voluntad pedagógica pero

qué nos aporta todo este debate a dónde nos lleva al final

no les va a gustar lo importante no es intentar borrar la presencia de una institución en un territorio

de lo que pueda suponer la administración general del estado y competencias compartidas o gestión compartida en la comunidad autónoma del país vasco intentar borrarlo para defender y para apuntalar una determinada posición política lo verdaderamente importante es qué servicio y cómo lo prestamos al ciudadano de qué herramientas nos dotamos para

familiar social también del territorio óptimo y que además nos permita ser competitivos en un mundo cada vez más complicado y en un mundo cada vez más difícil esa es la vocación con la que el partido popular asiste a este tipo de debate nosotros queremos pensar en el futuro

para afrontar ese futuro y para competir como les digo en un mundo que se transforma en una realidad que se transforma porque oigan hay una cesión permanente de competencias y soberanías de los estados tradicionales de los estados por ejemplo de miembros de la unión europea a instituciones comunes de la unión europea ustedes ven a dirigente políticos

del vaciamiento competencial no hay una voluntad de compartir y de cooperar

hay una cesión permanente no solo de competencias sino de soberanía de los estados miembros

no es en paralelo es contrario al que estaba habiendo en europa aquí la queja permanentemente es oiga yo no gestiono esto y quiero gestionarlo

de las competencias que disponemos porque oiga si viviéramos en una arcadia feliz en la que nuestro principal problema fuera que no tenemos la competencia de prisiones

el desarrollo económico y social de euskadi bueno pues pudiera ser un debate razonable pero es que mire fíjense tenemos una radio televisión pública

que hay un convencimiento generalizado de que no funciona y ahora hemos creado una ponencia para su mejora para su modernización

tenemos debates de fiscalidad en la que el propio gobierno vasco señor consejero no se pone de acuerdo con las diputaciones forales en materia fiscal tenemos los impuestos más altos de toda españa y resulta que aquí

hay que hablar de otras cosas de otras competencias tenemos un problema notable en materia educativa no cumplimos con los ratios sino desde luego no somos capaces de exprimir el importante potencial que tenemos para formar a nuestros chicos y a nuestras chicas resultan que nos lo tienen que decir también no solo nuestras valoraciones internas sino que nos vienen de fuera

el debate el debate es otro tenemos las políticas activas de empleo que por cierto

resulta que ya tenemos la competencia en las políticas activas de empleo señores de podemos lanbide

fue creado pero no hay que hablar de otras competencias resulta que oiga tenemos una policía integral como es la ertzaintza

pero el problema es otro el problema no son los conflictos laborales en la ertzaintza el problema no es el servicio que es capaz de prestar la ertzaintza por cierto con magníficos profesionales sino que hay que desviar la atención

han conseguido los nacionalistas centrar en el debate en la competencia cuando lo que debemos de hacer es centrar el debate en la incompetencia de la gestión en aquellas cuestiones que tenemos que mejorar sobre las que sí tenemos capacidad de actuar y una capacidad verdaderamente notable nosotros queremos centrar el debate en cómo prestamos un mejor servicio a los ciudadanos no

del estatuto de autonomía oiga vamos a participar en la ponencia creada al efecto vamos a participar y además con verdadero interés y determinación en la ponencia creada para analizar el estatuto de autonomía y ver las posibilidades de mejora estamos dispuestos a explorarlas

del estatuto de autonomía el debate tal y como ustedes permanentemente lo plantean es en otros términos el terreno de juego

no es ese es otro es el de los nacionalistas para nacionalistas será un debate y un planteamiento muy legítimo

pero no es un debate en el que los demás tengamos que entrar con sus reglas de juego no tenemos por qué entrar en los debates de si estamos homogeneizados

ha sido capaz gracias al estatuto de autonomía primero que tenemos las competencias más altas de la unión europea de cualquier región de cualquier comunidad de cualquier ente

de la comunidad europea y me atrevería a decir del mundo lo es lo es y desde luego expertos que

tenemos el mayor nivel competencial de occidente señorías así con rotundidad no si ya sé señor egibar a usted no le interesa hablar de las competencias que tenemos le interesa hablar de otras cosas

claro pero ustedes lo plantean no en términos de cómo hacemos para mejorar lo que tenemos y cómo hacemos para ser más eficaces y cómo hacemos para que los ciudadanos vascos y las ciudadanas vascas tengan más oportunidades

se reconoce suficientemente nuestra diferencia oiga es que el nuevo estatus

es el problema qué hacemos con las competencias de las que disponemos qué servicio prestamos al ciudadano

es verdad de verdad que ustedes creen honestamente que el problema para el desarrollo económico y social de euskadi es que no tengamos la competencia de prisiones de verdad lo están diciendo esa es las miras y la ambición que tienen ustedes de país

para hacer balance de gestión y para dar cuenta entre los ciudadanos nosotros no lo compartimos no lo compartimos

las potencialidades del estatuto estamos dispuestos a colaborar en mejorar las condiciones de los vascos lo que no estamos dispuestos y se lo anunciamos desde ya

es a aceptar una vez más el terreno de juego y las reglas que ustedes permanentemente marcan porque no son

para el debate político y para los tiempos que corren muchas gracias eskerrik asko sémper jauna erantzunen txandara pasatuz iriarte andrea zurea da hitza

pero lo que les queremos decir es que nosotros trabajamos para mejorar el futuro de este país ustedes marcan otras reglas que también son muy legítimas

pueda tener un futuro mejor del que tiene que en gran medida es porque no nos dejan avanzar en ciertos sentidos

para que sigamos discutiendo y dando vueltas al mismo tema

bien yo después de oír todas las intervenciones insisto en mi idea de que no entiendo

el motivo de que ustedes hayan presentado esta moción quiero decirle una cosa no es obligatorio porque se presente una interpelación

por si ustedes han pensado que tenían que hacerlo así verdad no tiene nada que ver pero

no hay soberanías compartidas las soberanías no se comparten ha dicho usted

ojiplático porque aquí en euskadi en nuestro país este país este gobierno comparte soberanía con las diputaciones forales con los territorios históricos comparte

y compartimos con el resto del mundo en todo lo que sea aplicación de la legislación internacional pero qué mundo sería este si jugáramos en una liga de soberanías excluyentes qué llegábamos al aislacionismo a lo que preconiza el señor trump al que por cierto ustedes felicitaron efusivamente cuando ganó las elecciones

el modelo que nosotros tendríamos que aplicar aquí yo creo que la enmienda que hemos alcanzado con el partido nacionalista vasco y con podemos que es una enmienda muy de sentido común

para constituir la ponencia de autogobierno y que ustedes básicamente compartieron porque no votaron en contra de la misma y se viene a reiterar y

esto que recalcaba aquí el señor martínez de la articulación social de euskadi de la extensión de derechos de la articulación

pero mucho mucho mucho a la que registró en esta cámara el partido socialista hace un año entonces bien está que tengamos puntos importantes en común entonces pongámonos a lo que interesa que es comenzar cuanto antes los trabajos de la ponencia y ese es el foro

o quien asista a la comisión por parte de su grupo para plantear todas aquellas materias relacionadas con el autogobierno vasco hacia dentro y hacia fuera

de intentar llegar al acuerdo lo más amplio posible lo demás pues son discursos que yo entiendo que ustedes tienen que hacer que les parece importante remarcar perfil político pero que tienen poco que ver con lo que hace
acordamos en este parlamento que es trasladar esos debates con todo lo que ello conlleva a la ponencia de autogobierno eskerrik asko pastor jauna egibar jauna zurea da hitza

en la réplica señor egibar ha sido el que usted ha manifestado sobre la seguridad social lleva siendo deficitaria en euskadi desde hace diez años un déficit de dos mil millónes de euros al año

todo el mundo sabe no cobran sus pensiones solo por una solidaridad intergeneracional

interterritorial y a usted en el relato este se le olvida muchas veces esto reconocer

que afortunadamente los pensionistas vascos cobran sus pensiones gracias a la solidaridad del conjunto de los españoles esto es una realidad objetiva

y esto es fruto de la colaboración y esto es fruto de vivir juntos

cómo es posible que en europa nos parezca bien la cesión de soberanía y no nos parezca bien

que este problema no es de quién tiene la competencia o no sino de cómo hacemos para gestionar mejor y hubo un momento determinado en que hubo un pacto político en el conjunto de la unión europea

virtud del cual se decidió qué camino emprender hay muchos antecedentes sin duda pero en las últimas décadas son estos pactos que se han ido materializando de cesión de soberanía

sino desde el convencimiento de que juntos vamos mejor señor egibar este es el

buscar cómo ser mejores cómo ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos cómo generar más oportunidades

cómo generar más oportunidades para el desarrollo económico y social también de un territorio

aquí y es el debate que usted permanentemente se empeña en refutar también es una posición política obviamente legítima pero es una posición

verdaderamente caduca o que desde luego no va con los tiempos y decía usted claro no se ha respetado la ley por parte del gobierno de los gobiernos entiendo sucesivos de españa bueno esto no es cierto

la discrepancia que lleva a una institución a un gobierno por ejemplo el gobierno vasco podría ser

no es una falta de respeto a las competencias forales es un choque o una manera de interpretar de una manera diferente por ejemplo la ley y usted no sale a esta tribuna diciendo o no sale el diputado general de turno oiga hay un vaciamiento de competencias de las diputaciones forales hay falta de respeto del gobierno vasco no

constitucionales los órganos para empezar una comisión mixta como usted bien sabe y luego un órgano cuando no se llega a un acuerdo un órgano jurisdiccional como les pasa a los ciudadanos que cuando no tienen un acuerdo buscan un juez que resuelva sus discrepancias esto para usted es falta de respeto entonces la falta de respeto desde cuándo llega o desde cuándo está después de que arzallus

el hombre de estado que nunca se ha avanzado como con aznar es a partir de ahí

es a partir de la transferencia por ejemplo de la pasada legislatura de numerosos impuestos indirectos cuándo es cuándo cifrará usted esta falta de respeto a la ley que no funciona así señor egibar que esto no es o se hace lo que yo quiero o me llevo el balón porque es mío que esto no funciona así

ponemos el acento en las sinergias cómo intentamos resolver los problemas entre todos

a otro para mantener una posición política determinada y terminaba yo creo le he creído entender cierta amargura cuando usted decía no hay tensión en la calle en la defensa del estatuto de autonomía claro es que la gente está tensionada por otras cosas la gente en la calle está tensionada porque quiere llegar a final de mes

la gente está tensionada porque quiere que se destinen y se ejerzan bien los recursos públicos

a ser posible pagar los mismos impuestos que pagan en burgos por ejemplo señor consejero pagan menos impuestos que es lo que sucede en el resto de españa no más eso es lo que a la gente le gusta tener una educación saber que a sus hijos le escolariza y que puede tener un nivel competencial y que además sale de esa escuela pública bien formados que se les dota por ejemplo de conocimiento de inglés la gente está tensionada con esas cosas es verdad yo lamento su amargura porque la gente no está tensionada con el estatuto de autonomía claro

la gente quiere que independientemente de quién ejerza las competencias se ejerzan bien y la gente quiere políticos responsables y gobiernos sensatos

y por esta línea no vamos muchas gracias eskerrik asko

que mata callando mata a los callados a los condenados al silencio y al olvido de ellos sabemos todo los expertos los pobrólogos los estudian

en qué trabajan cuándo trabajan qué no comen cuánto no comen cuánto no pesan cuánto no miden qué no piensan qué no votan en qué

por qué los pobres son pobres será que los pobres son pobres porque su hambre nos da de comer y su desnudez nos viste qué sería de nosotras

he querido empezar esta intervención compartiendo una pequeña parte de un poema de galeano

porque creo que aunque es duro como las vidas de muchas personas nos ayudará a empatizar con la urgencia

de poner la lucha contra la pobreza en un primer plano y de hacerlo de un modo coherente porque en una sociedad que quiere avanzar es urgente hacerlo sin dejar a nadie atrás

estos cambios y el hecho de que a día de hoy no haya plan de inclusión que sea hacen que sea primordial perdón como parlamento vasco señalar al gobierno con esto como una prioridad porque nuestras instituciones tienen un problema de coherencia si promueven el reconocimiento de derechos de personas pero no hacen el correspondiente esfuerzo para asegurar el buen funcionamiento de los servicios encargados de que esos derechos se hagan efectivos

porque una apuesta seria de lucha contra la pobreza implica ver la pobreza más allá de la exclusión social severa porque no solo afecta a una parte residual de nuestra sociedad

la pobreza se ha hecho un hueco en nuestras familias y en nuestros barrios las estadísticas retratan a la señora mayor

a la mujer que se hace cargo de ella sola de sus hijos al joven desempleado que no puede emanciparse y sigue dependiendo de sus madres y padres

a niños y a niñas cuyos progenitores son de origen extranjero al hombre que cada noche busca un lugar seguro para dormir en la calle la pobreza afecta a muchas personas todas ellas sujetos de derecho para todas ellas trabajamos para todas ellas tenemos hoy aquí traemos hoy aquí este debate

la pobreza fenómeno multidimensional afecta de distinto modo a muchas personas y también en euskadi afecta a parte de su ciudadanía voy a dar algunos datos que son fundamentales para tomar conciencia de la extensión y la intensidad de la pobreza en el oasis vasco euskadi tiene un índice de desigualdad que no para de crecer un incremento de cuatro puntos entre dos mil ocho y dos mil catorce

que este año no podrán poner la calefacción tres mil setecientos más que el año pasado

y casi otro dieciocho por ciento en riesgo de exclusión hay un dieciocho por ciento son muchas personas de ellas

han entrado en riesgo solamente en el año dos mil quince hay más de ochenta y uno mil personas que sobreviven con ingresos inferiores a trescientos treinta y dos euros mensuales

estos datos no me los invento son datos de la encuesta de pobreza y desigualdad social del gobierno vasco

de un incremento de la desigualdad de entre niños y niñas de rentas medias y bajas en euskadi ocho coma tres puntos en pobreza relativa cinco en la severa

en las familias de origen extranjero en euskadi también hay un nueve por ciento de niños y niñas en situación de pobreza severa cuatro de cada diez de origen extranjero también hay un treinta y cuatro coma cinco por ciento de personas pensionistas

que tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza es especialmente grave la situación

que reciben pensiones inferiores a los cuatrocientos euros al mes

que por mucho que digamos no llega a todo el mundo son datos para tomarnos esto

y diferentes políticas y herramientas herramientas que en muchos casos no están funcionando los planes las estrategias en opinión de este grupo parlamentario son herramientas que nos ayudan a mirar lejos para andar con un paso más certero

conocemos el plan de inclusión vigente y sabemos que no ha funcionado por lo que consta en la evaluación intermedia que se hizo del mismo en el año dos mil catorce

este parlamento acordó pedir al gobierno vasco y cito textualmente presentar antes de finalizar el primer trimestre del año dos mil quince

con agentes sociales y sindicatos a fin de complementar el sistema vasco de protección hoy traemos esta iniciativa a la cámara porque ese acuerdo fue incumplido por el gobierno

como si esta evaluación no lo hubiese puesto en cuestión o como si este acuerdo nunca hubiera existido pero aun más grave

reconocía que la elaboración del plan y su evaluación son un imperativo legal para este gobierno es una pena que a la consejera no parezca

el consejo vasco de inclusión social debe valorar la propuesta que remita el parlamento sobre este plan y a fecha de julio de dos mil quince dicho proceso aún no se había abierto

yo creo que ya es hora por eso hoy presentamos esta iniciativa

contempla el desarrollo de la estrategia integral contra la pobreza y entendemos que como elemento de control al gobierno que somos en este parlamento nos toca darle a este un tirón de orejas entendemos que

y a la estrategia contra la pobreza este gobierno ha manifestado una clara desidia pero algunas no hemos llegado a este parlamento para dar tirones de orejas asumimos la responsabilidad de dar un impulso a estas cuestiones

y poner la pobreza en el centro de la agenda política y con eso es suficiente

a las personas que lo están pasando mal entendemos la estrategia propuesta como una parte de este plan de inclusión

que marca objetivos que deben buscar con sus pasos la erradicación de esta lacra la erradicación de la pobreza

sino porque la sociedad vasca tiene los recursos para no tolerar

que esa realidad de injusticias se perpetúen es complejo sí pero no es imposible

es una cuestión de voluntad política eta jakin badakigu jaun andreok

posiblemente no tenemos su conocimiento jurídico ni el bagaje de haber estado tiempo en este parlamento seguro que en este debate se nos escapan cosas ya se procurarán

pero también tenemos claro que eso pasa porque somos gente normal nosotras venimos de la calle de trabajar cincuenta horas a la semana

de despedir a nuestras amigas en el aeropuerto porque ya no les queda esperanza

por eso sabemos que hay cosas que no funcionan bien

es urgente y esa gente no siempre tiene la misma capacidad de organización

sabemos que la pobreza que entra cada día en más hogares es urgente abordarla y es urgente hacerlo ponernos a trabajar desde el acuerdo desde la construcción y con ese objetivo como prioridad no es posible que el plan de inclusión siendo una prioridad para el departamento que ya ha comprometido su presentación

qué hacen las personas mientras tanto nosotras ojo reconocemos la capacidad que ha tenido euskadi aunque no solo su gobierno sino en gran y mayor medida sus gentes y sus luchas para paliar las consecuencias más graves de la pobreza y precisamente por esto proponemos más creemos que es fundamental apostar por una estrategia integral

en elkarrekin podemos vemos claro que hay posibilidad como también lo ven grupos de expertos y expertas que plantean que erradicar la pobreza en euskadi es posible directamente les pregunto hay voluntad

hagámoslo cuenten con nosotras sé que hoy nos van a contar ustedes que en datos pobreza estamos por encima del estado pero espero que eso no les lleve a conformarse

están pasándolo mal y no se conforman necesitan nuestra solidaridad pero es que además tienen derecho a contar con ella porque

la creación de empleo en sí misma no tiene por qué ser una herramienta para paliar la pobreza o acortar los derechos de desigualdad en una sociedad

así lo planteaba hasta ahora y tal y como demuestran sus propias evaluaciones ha resultado claramente insuficiente

que la creación de puestos de trabajo o el crecimiento económico de forma aislada y sin otras políticas y medidas no tienen por qué ser sinónimo ni garantía de prosperidad o bienestar del conjunto de la población en este sentido entiendo

damos un paso adelante y por ello quiero agradecer la generosidad de todos los grupos y la capacidad de llegar a un acuerdo como el que hoy demostramos aquí

contra la pobreza dentro del plan de inclusión que es verdad que el departamento comprometió a presentar pero marcando un plazo concreto de diez meses no son aceptables más retrasos dilaciones o esperas porque esto

pero sobre todo porque las personas no deben asumir las consecuencias de algo

además dicha estrategia habrá de partir de lo contenido en la evaluación intermedia

para poder identificar las debilidades y fortalezas de los dispositivos de lucha contra la exclusión cosa que entendemos en el año dos mil diecisiete debería estar más que hecha debatida aclarada y corregida

nuestra enmienda transaccional emplaza también al gobierno a desarrollar estas acciones garantizando los mecanismos de coordinación interinstitucional sin los cuales este trabajo sería imposible

incluso con la participación de las propias personas afectadas por la pobreza porque su voz es importante y porque así lo proponen

la inclusión social en euskadi ya desde el año dos mil catorce

contemplando la perspectiva de género porque sabemos de sobra que la pobreza tiene rostro de mujer y por lo tanto hay que pensar en nosotras y contar con nosotras

una inclusión viable para todas las personas apostar por un sistema de inclusión fuerte y adaptado a las necesidades de la población vasca es apostar por contar con herramientas necesarias

multidimensional y tendemos nuestra mano para trabajar en este parlamento y con este gobierno desde el lugar que ocupamos ya que entendemos que todas las miradas enriquecen y son necesarias

si hay acuerdos que vuelven a quedarse solamente en el papel sabemos que es necesario y urgente abordar dicha estrategia mediante un consenso que nos permita trabajar y apostar por dar un lugar digno en esta sociedad a todas las personas también

hoy estamos dando un paso creo que toca felicitarnos por ello horregatik bagoaz posiblea delako justua delako eta ezinbestekoa delako

pobreza las personas en situación de exclusión en riesgo

de inclusión activa que son una previsión de la propia ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social actualmente está

y sí que es cierto que este gobierno no ha sido diligente yo creo que es una cuestión que hay que ponerla hoy de manifiesto en este pleno en relación a bueno este gobierno mejor dicho

parlamentarios concretos y en propuestas de resolución aprobadas en esta cámara a propósito de múltiples debates que hemos tenido en esta materia

señora guanche especificarle que como nosotros bueno por lo menos el grupo popular y me imagino que así el resto

personas pegadas a la realidad de la calle pues cuando se han sustanciado estos debates en esta cámara hemos traído

subrayar que muchas de ellas han salido por acuerdo entre ellas la propuesta de resolución concreta en el debate monográfico que se sustanció como usted muy bien ha señalado el siete de noviembre de dos mil catorce para que la ejecutiva elaborara un nuevo plan de inclusión activa

de objetivos de líneas de actuación concretas y sí leemos

que se señala es la inclusión efectiva se habla de inclusión efectiva como uno de los objetivos

de inclusión social se habla concretamente de las personas empleables en situación o riesgo de pobreza y exclusión social que no reciben los servicios de empleo

perpetuándose en situaciones de vulnerabilidad nik uste dut hau helburu hau eta

al incumplimiento de los propios objetivos o las propias líneas estratégicas con todas las medidas de actuación puestas en marcha en relación al tercero plan de inclusión activa no lo décimos nosotros

del plan de inclusión activa en sus recomendaciones habla claramente

y estrategia para la inclusión social activa habla claramente de rehacer el diagnóstico en el que se basa el plan de inclusión social activa

debilidades y fortalezas habla también de reformular a partir de ese diagnóstico que hay que volver a hacer los objetivos estratégicos y generales del plan y también habla de establecerse también actuaciones concretas en relación a ese nuevo diagnóstico y a esa reformulación de y también se habla que deberá valorarse también la posibilidad de establecer por parte de las administraciones públicas nuevos servicios programas actuaciones que permitan alcanzar los objetivos señalados es decir en la propia evaluación intermedia también se señalan una serie

señales de alarma en relación al incumplimiento de los objetivos formulados en dicho plan de inclusión activa como decía no es la primera vez porque no somos extraterrestres señora guanche y como somos políticos desde luego los del partido popular

lo hemos constatado al principio de esta legislatura trayendo a este debate a esta cámara a debatir iniciativas concretas que tienen que ver con los problemas reales de los ciudadanos como son

ante la ineficacia de lanbide en la inserción socio laboral laboral de las personas que están percibiendo la rgi como también hemos traído a esta cámara

elabore en colaboración con otras instituciones un plan interinstitucional por el empleo que fue además aprobada en esta cámara

las evaluaciones realizadas tener en cuenta akordioak hemen ganbara honetan sinatutako akordioak y en ese sentido también quiero señalar ya

en el año dos mil trece el debate monográfico para hacer frente a la pobreza con propuestas de resolución concretas

al acuerdo en la que sin duda han sido también incorporadas las previsiones que conteníamos partido popular en nuestra enmienda en relación a este tema nosotros sí que consideramos que el empleo debe ser la máxima prioridad del ejecutivo y que el empleo es la mejor política social y por eso en dichas propuestas de resolución

algunas de ellas aprobadas una parte importante de dichas propuestas aprobadas en una de ellas se hablaba de favorecer

que también es una de las cuestiones que se han incorporado en esta enmienda de transacción hablábamos de medidas específicas para colectivos que tienen especiales dificultades hablábamos de dar a los demandantes de empleo una asistencia

hablamos de mejorar la eficacia y eficiencia de lanbide de subsanar sus deficiencias hablábamos de la implementación de itinerarios personalizados de inserción yo creo que esto es una de las asignaturas pendientes

creo que hay que profundizar y hay que reforzar todo lo relativo a estos itinerarios personalizados de inserción hablábamos de incrementar los ratios de intermediación hablábamos de planes especiales para la pobreza y exclusión

del acuerdo que ya se aprobó en esta cámara y sobre todo hablábamos también de diseñar medidas porque me parece importante también aquí no resaltar las medidas a posteriori sino también

poderes públicos desde un ámbito previo y diseñar medidas encaminadas a la prevención detección y atención de las situaciones de riesgo y exclusión social

las propuestas que planteamos en el anterior pleno monográfico y algunas de ellas fueron incluidas en las propuestas de resolución finalmente aprobadas

al acuerdo alcanzado hoy por todos los grupos con representación en esta cámara y finalizo señora presidenta en la que ponemos deberes al gobierno akordio honetan

betetzea le pedimos diseñar una estrategia integral contra la pobreza contenida en el plan de inclusión dos mil diecisiete dos mil veintiuno que como he señalado está pendiente el cumplimiento de los acuerdos monográficos del pleno monográfico

pedimos también incorporar en dicho plan las evaluaciones intermedias y la evaluación final cuestión que nosotros hemos hecho mucho hincapié en este negociación y finalmente también se ha incluido como he hecho antes referencia

la previsión o el mandato concreto de que se adopten medidas para favorecer la inserción laboral

bukatzea edo behintzat bakarrik o por lo menos

más debates en relación a esta cuestión porque el gobierno sea diligente en el cumplimiento de los mandatos parlamentarios y en todo caso que si sustanciamos debates en relación a esta cuestión sea para evaluar también concretamente qué ha hecho el gobierno en relación a los planes de inclusión activa y a todos los mandatos
en relación a estas cuestiones en esta cámara besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

muchas gracias presidenta debatimos hoy en este punto

no de ley del grupo elkarrekin podemos relativa a la puesta de una estrategia de erradicación de la pobreza la pobreza y la exclusión social son el resultado de un proceso complejo y multidimensional el ciudadano aislado no puede hacer frente a esa situación por eso para combatir la pobreza y la exclusión social

una acción conjunta de todas las políticas públicas y no exclusivamente desde la política social la relación del sistema vasco de servicios sociales con el empleo

que tales servicios sociales tienen en las personas trabajadoras posibilitándoles el acceso y permanencia en el mismo al procurarle las prestaciones que necesitan

al facilitarle los servicios sociales que les cubren

a las necesidades básicas en unas condiciones dignas evitando así que en riesgo de exclusión o excluidos socialmente en el marco de la lucha contra la desigualdad y a favor de una redistribución justa de la riqueza

que es la renta de garantía de ingresos un sistema que ha de evolucionar

económica en eso todos los grupos estamos de acuerdo el sistema de garantía de ingresos renta de garantía de ingresos prestación complementaria de vivienda y aes

que previene el avance de expresiones más graves de la pobreza contribuyendo a mantener en niveles más bajos los indicadores de percepción subjetiva

de presencia del fenómeno de la pobreza casi el cuarenta y dos por ciento de los ingresos totales de las personas afectadas por la pobreza en euskadi proceden del sistema de rgi prestación complementaria de vivienda y aes

de garantía de ingresos debemos de tener en cuenta que es el último eslabón de la cadena solidaria al que acceden los ciudadanos cuando no pueden conseguir un empleo o incluso aunque lo tengan cuando sus salarios o pensiones no permiten

vivir dignamente es un sistema de cohesión social indiscutible que permite paliar las consecuencias de la crisis en nuestra sociedad empleo y lucha contra la

son asuntos que están íntimamente relacionados hoy en día se puede estar en situación de exclusión social aun teniendo empleo la temporalidad los contratos a tiempo parcial salarios más bajos tras la reforma laboral del dos mil doce la brecha salarial

la precariedad laboral son unos de los principales factores a la pobreza me alegro que el grupo nacionalista

vascos el grupo eh bildu y el grupo

hayamos sido capaces de llegar a esta enmienda transaccional

la pobreza el grupo popular aunque no la ha firmado ya ha manifestado que votará a favor de la misma creo que esta propuesta transaccional es importante hoy hemos conseguido

a aglutinar los diferentes puntos porque además es una enmienda transaccional bastante extensa donde se recogen importantes cuestiones en primer lugar se hace referencia a que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a diseñar una estrategia integral contra la pobreza contenida

y que esta lo presente ante la comisión de empleo políticas sociales

plazo máximo de diez meses el parlamento vasco en segundo lugar insta al gobierno vasco a cumplir los acuerdos pendientes en el monográfico

de noviembre del dos mil catorce fruto del debate sobre la estrategia integral

y la pobreza así como a integrar las cincuenta y cinco recomendaciones contenidas

del plan vasco de inclusión social y eso es importante como ya se ha puesto de manifiesto

aquí porque muchas de esas recomendaciones que se recogían dentro de las conclusiones y resoluciones del monográfico no

transcurrido y en tercer lugar el parlamento vasco insta al gobierno vasco a adoptar las medidas necesarias para favorecer la inclusión socio laboral en todas las personas con riesgo de exclusión social y también que en

sociales como puede ser el ararteko plataformas y coordinadoras contra la pobreza tercer sector sindicatos y personas o colectivos de personas afectadas por la pobreza y además que en todo esto se mire

de género se tenga en cuenta la perspectiva de género cuestión también importante esta enmienda transaccional es por tanto muy completa hay que dar valor al plan de inclusión dos mil diecisiete dos mil veintiuno hay que meter

y debe abordar los cambios y actuaciones que han de acometerse para facilitar los procesos de inclusión social y laboral en la comunidad autónoma así como también

activa esta inclusión activa identifica la centralidad del empleo como una de las principales determinantes de los procesos de exclusión social y es necesario

esa exclusión social de las personas desempleadas o con empleos precarios a través de una atención más especializada por parte entre otros de lanbide como servicio de empleo

además de gestionar las prestaciones sociales es importante pues

la actuación de lanbide en este campo debiendo mejorar la formación para el empleo y los itinerarios de inserción de personas perceptoras de prestaciones económicas hay que mejorar las cifras de intermediación conseguidas hasta ahora por este organismo ya que estas han sido realmente bajas

una buena red de cobertura social pero también hay que mejorar la inserción laboral fundamentalmente para que estas situaciones no se cronifiquen

realizado y también al grupo popular que aunque no la ha firmado votará a favor de la misma porque también ha participado

hemos consensuado entre todos los grupos políticos de la cámara señora guanche

los demás parlamentarios no venimos de marte somos personas que hemos nacido en la tierra

hemos crecido con los pies en la tierra y estamos también con las personas estamos también en la calle y conocemos los problemas de los ciudadanos y hemos defendido y defenderemos

contra la pobreza ya sé que a ustedes les duele que como son un grupo nuevo que no lo décimos los demás lo repiten ustedes todos

pero es que es así y eso no lo van a poder cambiar ustedes nosotros llevamos mucho tiempo ahí no somos nuevos y hemos venido haciendo política durante todos estos años y la vamos a seguir haciendo dicho esto

matiz a lo que ha comentado usted concluir de todas formas pues agradeciendo todo el trabajo realizado y yo creo que el esfuerzo ha merecido la pena porque la enmienda transaccional que hoy se aprueba aquí va repercutir en la mejora de esa estrategia

contra la pobreza que es tan importante para los ciudadanos y ciudadanas vascas nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak arregi andrea zurea da hitza

neurri aitzindariak eta garrantzitsuak ditugu martxan euskadin aspalditik nuestro grupo entiende la pobreza como un problema de la sociedad en su conjunto

por eso en euskadi se viene trabajando desde hace mucho tiempo en poner en marcha medidas para evitar

en la medida de lo posible la situación de desamparo y desprotección a la que se pueden ver abocadas estas personas euskadi es solidaria nos dotamos

avanzado y cercano a los modelos de los países más desarrollados de europa modelo que defendemos y continuaremos defendiendo porque con sus imperfecciones y márgenes de mejora ha permitido la cohesión social en euskadi apostamos por la sostenibilidad y viabilidad del actual sistema de protección lo cual

para que nuestros hijos e hijas puedan desarrollar similares fines en el mañana porque son personas que deberán tener a los mismos derechos que hoy gozamos o al menos ese debe de ser nuestro ideal

que en euskadi venimos trabajando a favor de la inclusión social y en contra de la pobreza no solo si nos comparamos con el estado sino con el resto de europa y con el mundo la tasa de riesgo de pobreza en euskadi es del diez coma nueve en el estado el veintidós coma uno la dobla

euskadi es el cuarto país de europa con menor índice de pobreza lo cual no quiere decir que tengamos que caer en la autocomplacencias pero los datos datos son además

y un último dato euskadi ocupa el octavo lugar del mundo respecto al índice de desarrollo humano

le pedimos al gobierno que se cumplan los acuerdos pendientes aprobados en el pleno monográfico sobre paro y pobreza celebrado en el año dos mil catorce

a las nuevas necesidades que se recogen en la encuesta de pobreza y desigualdades sociales de dos mil dieciséis que como saben el gobierno encarga cada dos años

el gobierno vasco ya ha puesto en marcha muchas de las iniciativas aprobadas como propuestas de resolución en el año dos mil catorce

a la pobreza energética algunas medidas exigían la modificación del sistema de protección social que

para acometer dicha reforma desde el sosiego y el consenso como hemos venido repitiendo asimismo

imprescindible adaptar aquellas solicitudes a las nuevas necesidades y contexto actual que se desprenda de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales dos mil dieciséis porque igual

se pide al gobierno que dicho plan contenga medidas para favorecer la inserción socio laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social porque entendemos

estamos convencidos y convencidas del efecto integrador que tiene el empleo su importancia para luchar contra la exclusión social y la pobreza pero es necesario además avanzar un paso más y que el empleo que se genere sea de calidad como decía ayer mismo la propia sailburu por eso

con medidas encaminadas a la formación de estos colectivos centros especiales de empleo empresas de inserción

en cierta medida para contratar a personas que se encontraban en situaciones de especial vulnerabilidad y dificultad de acceso al empleo eusko jaurlaritza ez da geldi egon erabakiak

expuestas con motivo de la celebración del día internacional para la erradicación de la pobreza que hicimos nuestras por compartirlas y que reiteramos hoy por continuar siendo de máxima actualidad entre ellas decía el ararteko el señor lezertua

existen familias en situación de pobreza y hay muchas familias en riesgo de exclusión social afortunadamente euskadi dispone de una red de protección social que si bien no cubre la totalidad de las necesidades existentes produce el efecto de situar en niveles inferiores a la media europea los índices de pobreza y siendo el dispositivo más importante de la citada red de protección social la renta de garantía de ingresos

dos mil catorce decía pensar decidir y actuar juntos contra la pobreza todas las instituciones y administraciones

han y hemos de estar comprometidos con la erradicación de la pobreza y de la exclusión social en euskadi hay que pensar decidir y actuar juntos y juntas

se ha de asegurar que el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social se mantiene y se cumple debidamente

la mejora de la eficacia y del funcionamiento de ese importante dispositivo cubriendo las necesidades asociadas a la vida digna de todas y cada una de las personas que viven en euskadi

hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece sino de la sociedad y como tal su solución no puede ser patrimonio de nadie sino responsabilidad

por lo tanto apelamos a ese mismo espíritu de consenso y de responsabilidad de todos y todas para continuar trabajando por las personas que peor lo están pasando y que corren el riesgo serio en muchos casos de caer en la exclusión

espero que todas seamos normales dentro de que la normalidad es un concepto muy relativo

yo quería referirme y perdonad si no he sido exacta por eso he querido subirme a la réplica porque quería aclararlo

llevamos poco tiempo en la política profesional y por lo tanto creo pienso o así siento que es posible que tengamos visiones distintas

y sobre todo porque algo de lo que yo ya en este corto tiempo me he dado cuenta es de que los tiempos y el trabajo en las instituciones en ocasiones

desde luego de lo que no te quita es de echar más de cincuenta horas semanales en resumen muchas de nosotras venimos de la precariedad y desde ahí quería trasladar el discurso y desde ahí entiendo que conocemos algunas cuestiones que nos toca traer desde las tripas sobre el empleo tal vez con las prisas del discurso no

en ningún caso hemos dicho que para nosotros el empleo no sea una medida esencial porque si no nos habríamos negado o habríamos discutido mucho más sobre el punto

en introducir la señora garrido lo que queremos decir es que por sí solo el empleo no elimina la pobreza no erradica la pobreza hay que apostar

hay que apostar también por otros muchos aspectos empezando como señalan entre otros los del acuerdo del pleno monográfico por un empleo de calidad tal y como ha mencionado la señora arregi pero eso con las reformas laborales que no parecer sino mandar a peor la situación de muchas personas

se lograría sin articular de la mano y de las capacidades que tenemos en euskadi otros mecanismos como los sanitarios los de servicios sociales vivienda o garantía de ingreso porque entendemos que el empleo ya no te blinda contra la pobreza

por tener un trabajo y para validar esto está el precariado creo que eso no es algo que entra en cuestión en este debate sin más eta bukatzeko como mencionaba nerea kortajarena las recetas de siempre en nuestra opinión

seamos valientes y busquemos otras formas de hacerlo la pobreza es una preocupación y en eso coincidimos con lo que ha mencionado la señora

una preocupación y una ocupación de toda la sociedad caminemos

y no me queda más que felicitarnos por haber sido capaces de llegar a este acuerdo seguiremos pendientes de que no se quede en papel mojado

de los debates y de los temas que se traen a debatir a esta cámara suscitan dudas en cualquier caso no creo que sea el caso

debate yo resaltaría el acuerdo el acuerdo al que hemos llegado todos los grupos

esta vez este gobierno sí cumpla los mandatos y este mandato en concreto que le pone deberes en relación a la remisión del nuevo plan de inclusión social y el cumplimiento de los acuerdos que están incumplidos del pleno monográfico

sí señora guanche para nosotros el empleo desde luego es la mejor política social y desde luego ahí donde tenemos oportunidad de ejercer la política y gobernar nuestras acciones van encaminadas a la consecución de dicho

indudablemente conseguir mejores empleos y de calidad es uno de los retos que tienen las diferentes instituciones públicas pero hay que también reconocer que con las políticas que se han

instituciones europeas pues estamos en la senda de la recuperación y que es el camino que hay que seguir y que profundizar en ese camino nik azpimarratuko nuke sinatutako edo

y por eso también a parte de traer una iniciativa concreta en relación a la elaboración de un plan interinstitucional para fomentar el empleo en la comunidad autónoma del país vasco en coordinación con otras instituciones también hemos traído

el debate de las deficiencias de los instrumentos que tenemos como es lanbide entendemos que aquí este gobierno tiene que cambiar de rumbo

y sobre todo con la actitud vigilante que vamos a tener algunos grupos y desde luego el partido

oportuno felicitarnos por el acuerdo alcanzado y sobre todo por el esfuerzo que hemos hecho todos en

beno eskerrik asko berriz ere pues de extraterrestres y

hemos tenido esa sensación alguna vez en esta cámara pero creo que

alguien tuviera una vena y tuviera capacidad de elevarse un poco y que pudiera ver los debates desde otra perspectiva porque eso siempre es sano entonces sea desde

desde un avión o desde otros ámbitos el poder analizar las situaciones

no me cabe la menor duda de que todas y todos los que estamos aquí tenemos una vida antes y después pues es también interesante y es la trayectoria que trae a cada uno hasta este parlamento pues también es interesante

que sí que sería importante que eleváramos el foco y analizáramos

yo tampoco y lo he dicho muchas veces puedo compartir que las mejores políticas sociales sean las del empleo

de las personas trabajadoras pobres ponen de manifiesto que ese paradigma está agotado eso no quita y no resta importancia al empleo no le resta ninguna importancia pero

ninguna estrategia de erradicación de la pobreza se puede centrar exclusivamente en ese camino o debe centrar la mayoría de sus esfuerzos en esos porque lamentablemente si algo tiene la pobreza es que multifactorial

y multidimensional y la verdad es que mencionando también los extraterrestres me gustaría invitaros bueno invitarles también a hacer un ejercicio y

que este acuerdo que yo pongo en valor si algo tiene

y nos hace ponernos en marcha conjuntamente porque nos guste o no de este tipo de cosas hablamos mucho pero hay veces que hacemos demasiado poco o lo que hacemos no tiene el impacto que debería tener y hay un ejercicio que es muy interesante que lo demuestra

en google la palabra exclusión o pobreza y van a imágenes aparecen un montón de imágenes sobre lo que es la pobreza y exclusión muchas imágenes que hay muchas veces que son un poco

pero que reflejan una realidad si hacen el mismo ejercicio

inclusión podrán ver que no hay imágenes reales que todas las imágenes que aparecen relativas a la inclusión son pues estos muñecotes que se agarran que van en una silla de ruedas

y que tal pero no son una realidad no son una realidad y es que la inclusión hoy por hoy no es una realidad es un deseo seguramente compartido

eso que no se ve lo que no se ve no existe y lo que no existe no entra en ninguna agenda política y lo que no entra en ninguna

y sobre lo que no se planifica no hay recursos para llevar adelante y en ese sentido si algo ha dejado en evidencia esta crisis es que hay un invisibilidad una invisibilidad de un montón de

en situaciones muy graves algunos en situación de exclusión después de la crisis pero otros y otras

pese a los esfuerzos no es una situación nueva horregatik iruditzen zait bide bezala oso akordio positiboa dela

señora guanche le agradezco sus matizaciones pero le insisto

grupos políticos hay personas que provienen de la precariedad laboral y otras que no en su grupo no todo el mundo proviene de la precariedad laboral que parece que en su exposición lo presentaba así hay personas en su partido político que provienen como pasa en el resto de partidos políticos de situaciones mejores

y situaciones peores y precarias ningún partido tenemos la exclusión de la precariedad laboral porque somos la suma de un montón de personas que provienen de la sociedad con un bagaje profesional previo que lo aportan a la política y vienen aquí

pero en eso todos los partidos tenemos una malgama diferente porque la sociedad en sí es plural yo

yo creo que hoy en el tema que nos ocupa hemos conseguido una enmienda transaccional importante una enmienda transaccional muy completa y además hemos llevado un trabajo previo concienzudo de contacto entre los diferentes grupos políticos que nos ha permitido llegar a recopilar

los cinco puntos recogidos en esta propuesta transaccional que van a mejorar y van a permitir mejorar en esta estrategia de lucha la pobreza tan importante teniendo en cuenta las situaciones de exclusión social que se han venido generando como consecuencia de la larga crisis económica en la que estamos inmersos y que evidentemente cada vez que pasa el tiempo los bolsillos de los ciudadanos

conocemos enormemente y desde luego es muy importante que desde la política se tengan en cuenta esas estrategias se actualicen se recojan dentro del nuevo plan para los próximos

y las conclusiones que se van a sacar de todo el trabajo

transaccional y yo creo que eso es lo importante y en temas tan trascendentales como este para todos los ciudadanos y ciudadanas vascas desde luego es muy positivo que exista una unanimidad

en buscar precisamente esas medidas y esas políticas para conseguir

de la pobreza lo antes posible nada más muchas gracias eskerrik asko

no nace con la iniciativa que hoy nos presentaba podemos todos como le recordaban

apegada al suelo conocemos a nuestra ciudadanía

lo que está ocurriendo y además llevamos años trabajando

y ahí están los datos que le leía en la primera intervención que nos sitúan en una situación buena o si se quiere para ser más correctos menos mala de los países europeos más avanzados evidentemente que no podemos caer en la autocomplacencia y es verdad como decía en el primer turno que la grave crisis padecida ha incrementado el número de personas que se encuentran en situación de ausencia de bienestar o en riesgo de exclusión e incluso en pobreza por ello

si fuera tan fácil como aprobar un plan y poner en marcha todas las medidas que en el mismo se recojan no existiría pobreza ni personas pasándolo verdaderamente mal ni en el estado ni en ciudades como cádiz madrid barcelona

ni en el resto del mundo señora garrido hablaba y decía que en las negociaciones ella el partido popular había hecho mucho hincapié en el tema de que se han de tener en cuenta las evaluaciones intermedias del plan anterior esto es una exigencia legal y es verdad que la insistencia del partido popular ha sido

a la totalidad presentada en su día entonces la importancia

aprobación unánime sí pero sin la firma del partido popular una vez más a pesar de haber recogido esa insistencia suya y su

que también se la ha recogido literalmente porque de hecho todos y todas estábamos de acuerdo en su

raca racas que nos suele hablar habitualmente pero mire a pesar de que usted siga insistiendo en que este gobierno no hace nada la ineficacia la falta

del sociómetro y donde la ciudadanía incluso aumentaba la confianza en el partido nacionalista vasco por tanto tan mal todo

erradicación del empleo y que no es el único en eso compartimos totalmente y además creemos

ha de ser de calidad y en eso venimos insistiendo en que no porque si no no existiría la pobreza laboral de la que hemos hablado también en muchas ocasiones

con la voluntad de todos los grupos de conseguir

remar en la misma dirección y buscar y ojalá encontrar entre todos y todas las medidas para solventar dentro de nuestras posibilidades y limitaciones

de ir mejorando la situación mila esker eskerrik asko arregi

egun on guztioi ciento cincuenta y seis guardias civiles ciento cuarenta y nueve policías nacionales quince asesinados en euskadi miles de heridos coches quemados ataques insultos a los agentes y a sus familias

apaleados en las fiestas de bilbao kale borroka amenazas ese fue durante demasiados años el día a día de las fuerzas y cuerpos de seguridad

hablamos de un nuevo tiempo y si podemos hablar de un nuevo tiempo es porque eta ha sido derrotada por las fuerzas y cuerpos de seguridad por el estado de derecho por la sociedad vasca y por el resto de la sociedad española podemos estar en un nuevo tiempo pero un nuevo tiempo que se parece demasiado en ocasiones al viejo tiempo en el que hemos visto el ataque a dos guardias civiles en alsasua solo por el hecho de serlo

hemos visto concentraciones delante de las comisarías

todo ello no ya sin la condena sino con la participación

este nuevo tiempo que tanto gusta proclamar a algunos no ha llegado para la izquierda abertzale

en el pasado en un pasado de complicidad con eta con todo el sufrimiento el dolor y las muertes

terrorismo que hoy siguen sin condenar asistimos a una involución a un estancamiento en la teoría del conflicto con el objetivo de blanquear ese pasado su pasado de connivencia con eta una teoría según la cual el terrorismo es solo una violencia consecuencia de un conflicto político

donde hablan del conflicto producido por motivación política y de elaborar un relato complejo e integral y habla de diversidad de opiniones el terrorismo

a la sociedad vasca y al resto de la sociedad española no es una cuestión de opinión es una realidad una cruel realidad

precisamente porque estamos en democracia existe

puede decir lo que dijo pero eso no quiere decir que los demás no podamos reaccionar ante sus palabras porque en sus declaraciones equipara la trayectoria de una banda terrorista como eta con cerca

con el estado de derecho equipara terrorismo con la actuación

del marco democrático y las libertades contra las que ese terrorismo ha atentado sistemáticamente estamos ante un paso más ante un ejemplo más de la vuelta al pasado de la estrategia de la coartada y la justificación de eta en la que están los dirigentes

textualmente dijo el señor otegi en este país ha matado eta el gal y el batallón vasco español

esto es sencillamente inadmisible este parlamento debiera posicionarse de manera clara y contundente en defensa de quienes precisamente

no podemos mirar para otro lado cuando nos encontramos con estas declaraciones que son

que no pueden admitirse después de todo el sufrimiento que hemos padecido en la sociedad vasca aquí ha habido terroristas y personas que han sufrido el acoso de los terroristas

que han sufrido la persecución de eta que han perdido la vida a manos de esa banda terrorista personas que han visto alteradas su forma de vida sus hábitos las de su familia los de sus hijos por culpa de eta que esas mismas personas tengan que soportar hoy que representantes políticos que pertenecieron a eta como otegi les equipare con los mismos terroristas que durante años

aquí ha matado eta ha matado el gal ha matado el batallón vasco español bandas de asesinos bandas de terroristas

han aguantado de manera ejemplar para combatir ese terrorismo han sido un pilar fundamental en la defensa de la libertad y los derechos fundamentales de los vascos

la de quienes durante muchos años se dedicaron a señalar y a jalear a los asesinos insiste en equiparar una pieza fundamental del estado de derecho

solo ha perseguido precisamente acabar con ese estado de derecho tenemos una responsabilidad democrática una exigencia ética de no pasar por alto estas afirmaciones que intentan equiparar a víctimas y a verdugos este parlamento tiene que ser un ejemplo

como decía antes en el pasado en falsear ese pasado terrorista y en su nula voluntad de reconocer el daño causado por eta a este país la guardia civil la policía nacional y la ertzaintza lo que han hecho es luchar han sido y son baluarte en defensa de la paz y la convivencia por lo tanto representan

a eta y a su trayectoria terrorista no pueden ser equiparados y es inadmisible que alguien pretenda equipararlos y tiene que denunciarse

en este parlamento y nuestras familias les debemos mucho les debemos la vida habernos dado protección seguridad para poder seguir viviendo eta

resistieron soportaron el dolor de tener que enterrar a muchos compañeros dejaron de cumplir con su compromiso en la defensa de los valores democráticos hoy aquí en este mismo parlamento hemos homenajeado a fernando buesa que fue asesinado juntos al ertzaina

y yo les pregunto quién ha asesinado en este país

quién ha asesinado en este país señor otegi quién puso

de fernando buesa y de jorge díaz acaso jorge díaz pertenecía a una banda de asesinos acaso no fue

mientras pretendía proteger de esos mismos asesinos a fernando buesa

el pasado de eta por intentar confundir por meter en el mismo saco a víctimas y a verdugos

un falso relato y nuestra obligación democrática tiene que llevarnos precisamente claro y meridiano ese pasado sin ambigüedades y sin equidistancias que en este país hubo y todavía hay una banda terrorista que mató

en esa primera línea de resistencia siempre estuvieron policías nacionales guardias civiles y ertzainas ellos persistieron en la lucha

con una determinación encomiable solo pedimos que el parlamento responda de igual manera que demuestre un gesto hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

que este parlamento tenga la misma determinación democrática que siempre ha guiado la actuación de policías

contra eta se los debemos a ellos y también al conjunto de la sociedad no podemos

asesinos y a víctimas no podemos darlas por buenas no reaccionar ante ellas no poner de manifiesto su gravedad estoy reclamando un gesto sencillo y claro pero de justicia democrática un gesto necesario tenemos la obligación de contraponer la verdad a la mentira y de no pasar por alto a quienes insisten en falsear el pasado terrorista de eta

de la ertzaintza jaleaban hasta hace muy poco que eta atentará contra los ertzainas que lanzaban amenazas

hoy tu de negro mañana tu mujer o es que ya

este parlamento no puede pasar por alto ni las declaraciones de otegi

porque en esa estrategia de construir un falso relato parece que ahora han colocado en primer lugar

con concentraciones delante de las comisarias concentraciones vergonzosas esta foto es la foto de una vergüenza de una auténtica vergüenza que todos debemos denunciar una muestra de hostigamiento

hostigamiento que llegó incluso al señalamiento como en el caso de joseba goikoetxea asesinado después de una campaña de herri batasuna contra él y hay que señalar también que hay que ser claros y contundentes

porque hay que decir también que de aquellos polvos llegan estos lodos

pero no solo por los de siempre sino también por el propio gobierno vasco se sienten abandonados por quien debieran defenderlos después de años luchando contra eta

de moralidad y de ética ha tenido que ver

y convivencia se le dedica una ficha específica sobre la necesidad

avancen en la defensa de los derechos humanos han tenido que ver cómo se ponía en entredicho el compromiso

incluidos en una misma lista de terroristas y asesinos han tenido que ver cómo se les exige cercanía con los ciudadanos como si alguna vez

y han tenido que ver también como no se impiden concentraciones a favor de terroristas en lugares donde se ha asesinado

en lo que es una absoluta falta de sensibilidad y respeto y aquí como dicen los propios agentes de la ertzaintza no se pude hacer

no se puede hacer borrón y cuenta nueva no se puede construir un falso pasado para permitir que algunos no tengan que enfrentarse a la vergüenza de qué hacían y dónde estaban en ese pasado la guardia civil la policía nacional

han contribuido siempre y durante mucho tiempo en un contexto condicionado por el terrorismo a la defensa de los derechos humanos por ello merece el reconocimiento y el agradecimiento de toda las sociedad vasca y las instituciones vascas palabras muy parecidas a estas que hoy yo acabo de decir las decía en esta cámara el lehendakari el señor

algo muy sencillo y algo muy claro que no permitamos esa equiparación y que hagamos ese reconocimiento a quien siempre estuvo en la lucha
por los derechos y la democracia nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

treinta y tres años que un trabajador vasco pedía la confianza de sus vecinos para volver a ocupar estos escaños y usar la palabra y hacer política

abrió la puerta de su casa y las únicas palabras que le dio tiempo a pronunciar

la papeleta electoral que encabezaba fue la de cobardes pero aunque mataron a enrique casas ese día días después aquella papeleta miles de guipuzcoanos y aun hoy hay quien no aprende

que los razonamientos que nos trae el grupo popular tienen una base fundada de hecho constatamos con mucha preocupación que las declaraciones a las que se refieren

ni una traición del subconsciente ni una mala interpretación periodística vienen siendo reiteradas y sostenidas en el tiempo en un indisimulado interés de la izquierda abertzale de querer ocultar el foco principal de la gran tragedia padecida en este país

con un hilo conductor que es la existencia de eta lo reconocemos

que no es acertado que desde el parlamento reprobemos declaraciones de dirigentes políticos con responsabilidad política sí pero que no tienen ningún cargo público ni institucional de hecho hemos escuchado recientemente y aquí mismo

que a una mayoría nos han removido los escaños y sin embargo tal y como ha llegado esa iniciativa no merecerían para ustedes ese rechazo no ha habido iniciativa concreta en ese caso

al escuchar al portavoz de bildu reivindicó expresamente que se pudiera oír lo que desde esos escaños se nos está pidiendo que con tanto dolor como queda por reparar

para eludir su responsabilidad y los socialistas compartimos esa preocupación

ante quienes quieren extender un manto de olvido y creemos que se lo debemos reprochar de forma permanente y directa a quienes se sientan con nosotros en estos escaños a quienes tienen la responsabilidad más que nadie en este momento con el conjunto de la sociedad de decir con nitidez que jamás nadie

asesinar torturar extorsionar o amenazar ni por razón de estado ni por imponer un proyecto político insistiremos con rotundidad en esas palabras hasta que los setenta y cinco parlamentarios que nos reunimos aquí y representamos a todos los ciudadanos

sin matices y sin retóricas hoy hemos comenzado este pleno recordando a dos compañeros del partido socialista que nos precedieron en esta cámara y que fueron injustamente asesinados y lo hemos hecho en silencio pero los socialistas no queremos

esconda las palabras para esconder vergüenzas a ese afán por disfrazar la verdad aludió expresamente fernando buesa la última vez que eta

para decir verdades como puños el dieciocho de febrero del año dos mil solamente unos días antes de que le asesinaran creo que apenas cuatro personas de las que hoy estamos en esta cámara

el propio lehendakari si no me equivoco el señor egibar el señor barrio

un par de semanas antes sí un par de semanas antes nada más que eta hubiera asesinado a pedro antonio blanco en madrid y romper aquello que se llamó

buesa desnudó la realidad de quienes se enfrentaban a la política desde bases éticas y democráticas

para tanta sinrazón no voy a entrar en discrepancias radicales de entonces porque supimos encauzar acuerdos que han sido transcendentales con posterioridad como la colaboración policial

el gran acuerdo para la ley que pretende reparar a las víctimas de todos los terrorismos la que busca empezar a reparar la de abusos policiales

donde todos queremos participar para gestionar todas esas políticas públicas de memoria unas políticas que supondrán porque no va a poder ser de otra forma

de todas las personas y sectores sociales y profesionales que han sufrido el terrorismo y otras vulneraciones injustas de los derechos humanos pero hay palabras

que diecisiete años después tienen la misma vigencia que entonces me van a permitir que en los próximos minutos cite palabras textuales de aquella declaración que hizo fernando buesa en enero del año dos mil

buscada deliberadamente por sus asesinos es un acto radicalmente injusto

porque el asesinato en modo alguno puede ser considerado un acto político por eso no basta solo con lamentarlo no basta si al propio tiempo no se condena también la mano asesina que le arrebató injustamente la vida sean cuales fueras las ideas políticas que cada uno defienda

ninguna idea ningún proyecto político es legítimo en un sistema democrático si se pretende imponer a los demás con violencia a costa del asesinato de nuestros conciudadanos o tratando de impedir también con violencia

y defensa de las ideas discrepantes para enfrentarse a ese enemigo y conjurar su amenaza es necesario expresar de modo claro y en términos políticos algunos principios es necesario evitar errores y es necesario también aunar esfuerzos afirmar en primer lugar algunos principios que al menos en nuestra opinión decía fernando son los siguientes

no puede ser considerada como una organización o un agente político equivocada en los medios pero aceptable en sus fines y objetivos matar extorsionar explosionar bombas no son en ningún caso actos políticos sino criminales

planifican o ejecutan no son ni gudaris ni patriotas ni héroes no merecen el homenaje de nadie sino la repulsa de todos eta nada representa que valga la pena para este país son otros quienes les otorgan esa representación cuando tratan de explicar de comprender de excusar

cuando consideran sus consignas o sus propuestas es un error

y política porque la política la política democrática ha de hacerse en paz no a cambio

por eso si tenemos en cuenta ese principio siempre es posible desde la deslegitimación desde la deslegítima discrepancia de proyectos actuar de común acuerdo

hasta aquí las palabras de fernando en enero del año dos mil cuando acababan de matar a una persona y cuando eta ya había decidido la propia muerte de fernando tuvo réplica aquel día sí

en esta misma tribuna decía el señor otegi al fin y al cabo

todos sabemos aquí lo sabemos muy bien además que aquí existe un conflicto político primera cuestión y que por tanto en esa batalla política de un modo u otro habrá que reconocer al país vasco la justicia y la democracia que le son debidas en definitiva el reconocimiento político del país vasco que el país vasco y su sociedad es sujeto de derechos políticos habrá que reconocer eso no sabemos cuándo cuanto antes mejor

mediante operaciones policiales militares técnicas porque cuarenta años así lo demuestran

se prolongó mucho más allá de una docena de años y el fin de eta no fue tampoco como predijo la izquierda abertzale se equivocaron ganaron los principios

y ganó la democracia que reivindicaba fernando que reivindicamos los socialistas y que reivindicamos la mayoría de los que estamos aquí por encima de cualquier violación de derechos cuánta vigencia tienen hoy en día las palabras de fernando cuánta insistencia de otegi en insistir todavía hoy

error pero las palabras del primero apelaban a toda la sociedad vasca las del segundo se dirigen solo a los suyos por eso han triunfado las primeras

y de la convivencia volverán a triunfar la ética los principios y la democracia no se borrará la injusticia de cada asesinato

por ello queremos reconocer una vez más a quienes han trabajado activamente

a los agentes policiales a los agentes políticos a los agentes sociales a todos los que han hecho posible que hayamos llegado hasta aquí y cuya tarea y también sus miedos
deben ser proyectados por gogora que es exactamente lo que pedimos en nuestra enmienda eskerrik asko pastor jauna

esta iniciativa solo pretende traer una cantidad ingente de barro para embarrar aún más un debate que ciertamente complicado y que nos va a conllevar muchas dosis de empatía y de confianza para poderlo trabajar sin embargo vuelvo a decir se vuelve a traer barro sobre el cual está claro que nada se puede construir todo el mundo sabe que

no es posible establecer cimientos sobre los cuales sustentar absolutamente nada los proponentes fijan nuevamente posición una posición que es conocida y una posición que interpretamos también

tal vez consideren que esta iniciativa es eficaz para asentar un discurso de vencedores o vencidos sin embargo de tantas veces traerlo de tantas veces apuntarlo consideramos que se duda realmente del arraigo que pueda tener este discurso en la sociedad si tanto foco precisa

de que esté calando y creo que la sobreexposición continua de este discurso acaba conllevando precisamente el efecto contrario que se busca cuál es el relato que se trae hoy lo expresó el señor basagoiti

unos años dijo eta ha asesinado

cero no sé si equiparó no sé si estableció bandos

lo que sí sé es que no es un problema de cálculo o un problema de recuento porque este recuento es falso

falso que se quiere imponer porque es un relato que obvia la realidad que obvia la verdad y que obvia la certeza de lo realmente ocurrido

leyó el listado de víctimas de eta escuchamos con respeto nadie negó nadie discutió nadie puso en duda

es cierto es verdad pero todos sabemos que aquel listado no es el único listado eta hori da pentsatzen dudana otegi jaunak

la semana pasada a cuenta de la proposición de euskal herria bildu sobre la salida de las fuerzas de seguridad del estado expliqué que en nuestro grupo creíamos que se trataba de una

un discurso de cara a la galería y traer algo a colación que sobrevuela de manera permanente todas las cuestiones de memoria y convivencia que es el archi manido relato en el pleno pasado utilizaba una imagen para describir la situación

pues no era la primera vez que en un corto período de tiempo hablábamos sobre el relato pues bien hoy

el partido popular nos deleita con lo que coloquialmente sería

hoy el partido popular nos trae el más difícil todavía nos propone como tema de debate

que ni tan siquiera es parlamentario de esta cámara hechas

y que por supuesto no compartimos no compartimos lo que dijo no compartimos esa visión de las víctimas entre las suyas y el resto pero de ahí a traer este tema

pero no vamos a hacerles el juego hoy en elkarrekin podemos vamos a centrarnos en volver a dejar constancia de nuestra posición respecto al relato y a una serie de cuestiones

y voy a cerrar la intervención con una constatación y con una invitación en primer lugar

es imprescindible que se reconozca a todas las víctimas sin excepción alguna qué significa esto afirmar que independientemente del tipo de violencia o de quién la ejerció todas las víctimas merecen nuestra solidaridad y respeto por su injusto sufrimiento

a la justicia y a la reparación y eso señores del partido popular para no caer en el nuestras víctimas o las otras víctimas

ustedes quienes tomen algunas iniciativas como por ejemplo modificar la ley de víctimas estatal para que reconozca a todas

solo haciendo esto únicamente así se permite a esas víctimas a todas las víctimas ejercer sus derechos

si decía al comienzo que es necesario reconocer a todas las víctimas sin excepción ese reconocimiento debe hacerse desde la especificidad de cada victimación qué quiere decir que efectivamente no vale hacer un interesado totum revolutum de todas ellas

y por extensión de victimarios que es necesario identificar analizar reparar y deslegitimar cada forma de violencia de manera específica

necesitan y merecen un abordaje propio y diferenciado pues el hecho de que un sector social amparase la violencia contra ellas hace que para promover la verdad la justicia y la reparación esto sea tomado en cuenta del mismo modo que las víctimas del terrorismo de estado hoy no han sido ni tan siquiera reconocidas legalmente que han sufrido la violencia por parte de aquel que debía precisamente protegerlas ese desamparo aún hoy existente debe ser abordado y reparado de una forma particularizada y lo mismo

en tercer lugar que la convivencia una convivencia democrática

si conseguimos asegurar que nunca más nadie crea que la violencia es un método político aceptable esa garantía de no repetición tiene como base precisamente algo en lo que hemos insistido ya unas cuantas veces la deslegitimación de todas y cada una de las violencias

el relato que necesitamos un relato que sea inclusivo de todos los sufrimientos un relato veraz

porque el hecho de ser inclusivo o compartido no puede ser excusa para que deje de ser riguroso históricamente un relato que tiene que permear a toda la sociedad

un relato que debe tener como base la deslegitimación de la violencia que diga alto y claro que matar está hoy mal y estuvo mal siempre asesinase quien asesinase igual que estuvo y está mal torturar y secuestrar y extorsionar o amenazar ese relato así entendido nunca debería serlo un arma arrojadiza

ese relato para ser útil eficaz o incluso posible debe ser necesariamente compartido no puede ser impuesto de ningún modo

debe haber vencedores y vencidos pero unos radicalmente distintos a lo que ustedes plantean yo les propongo que los vencedores sean los derechos humanos

la convivencia y un estado plenamente democrático y de derecho y que la vencida sea la violencia tocará a cada uno reflexionar y revisar críticamente su pasado

que se apoyó toleró amparó justificó negó minimizó o ante qué cosas se miró hacia otro lado

como he dicho antes voy a hacer una constatación y una invitación la constatación es que hoy se va a volver a evidenciar que hay una amplia mayoría política en este parlamento que en cuestiones de paz memoria y convivencia

cada cual sabrá y deberá explicar por qué no quiere sumarse a ese camino nosotras aunque echamos cosas en falta y a pesar de que expresaríamos nuestra posición en otros términos nos abstendremos a la enmienda presentada por el grupo socialistas vascos y la invitación es que si están interesados o si están interesados en debatir sobre estas cuestiones compañeros y compañeras del partido popular súmense a la ponencia sobre paz y convivencia y debatamos allí

por qué porque a nosotras a pesar de los desacuerdos que tenemos no nos sobra el partido popular no nos sobra de este país y no nos sobra para construir ese relato inclusivo y compartido sentémonos

porque a nosotros no nos sobra nadie la sociedad vasca la demanda y las víctimas lo necesitan eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

con un pronunciamiento sobre las opiniones públicas de nadie tampoco

que son derechos fundamentales y como tal deben tratarse así lo defendemos también en el caso de que esas opiniones nos parezcan criticables como es el caso también cuando nos parecen insultantes como es el caso

con toda claridad le décimos que las palabras que pronunció pretendiendo equiparar víctimas con victimarios

merecen nuestra crítica y las consideramos insultantes lo dijo el lehendakari urkullu y hago mías sus palabras tomo las declaraciones de arnaldo otegi como un insulto es un insulto a la ertzaintza y a la sociedad vasca un insulto a la ertzaintza histórica y su sucesora

en todo su sufrimiento y en los pasos que ha dado a favor de la convivencia normalizada a favor de las memorias de las víctimas de todas las víctimas del terrorismo y de la violencia

falseadoras de la realidad e hirieron a una gran mayoría de esta sociedad dicho queda y no hace falta repetirlo y ahora del dicho a los hechos

porque hemos defendido siempre que el parlamento no debe pronunciarse sobre las opiniones públicas de representantes políticos esa no es función del parlamento insisto que nos corresponde velar por la libertad de pensamiento y expresión y me acojo a esa libertad para reafirmar lo que considero más importante en este momento

porque habíamos sufrido mucho hasta entonces con las actuaciones represivas de otros cuerpos de seguridad las y los responsables políticos las y los miembros han tenido muy en cuenta la prioridad del respeto a los derechos humanos y lo han hecho siempre a pesar del intento de enfangar también hoy

pretende mejorar ir más allá en ese compromiso de la ertzaintza en ese compromiso fundacional

y lo han defendido a pesar del acoso y la persecución que durante años

emango balitu iragana zuritu nahian ibili baino compartimos con el partido popular su deseo de que el gobierno continúe impulsando con el conjunto de la sociedad vasca

es precisamente uno de los objetivos fundamentales del plan de paz y convivencia vigente y lo será también

de convivencia y derechos humanos es uno de los fines principales del instituto gogora es uno de los objetivos y trabajos que afronta la ponencia de memoria y convivencia es evidente que tenemos mucho que avanzar pero son la ponencia el debate sereno y el trabajo compartido los que nos harán avanzar por eso votaremos en contra de la proposición no de ley presentado así como

de la enmienda del grupo socialista nada más eskerrik asko eskerrik asko

gracias de nuevo señora presidenta bien se dice

que ha habido una sorpresa por la presentación de esta iniciativa que no tiene ningún

en primer lugar una carta que una señora escribió en cartas al director en deia

cuando no olvidadizo hablando de matar aquí en euskadi los que mataron a personas inocentes entre ellos muchos ertzainas con premeditación

son aquellos a los usted siempre ha defendido y aplaudido señor otegi si tiene un mínimo de dignidad

que día a día se levantan para hacer más digna y más segura la euskadi que usted habita

luego hay mucha gente en la calle que no entiende que se pueda equiparar a una banda terrorista con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado decía usted cuál era el objetivo de esta iniciativa

y la verdad ese es el objetivo de esta iniciativa y es absolutamente indigno absolutamente injusto y absolutamente falto a la verdad comparar la trayectoria de unos asesinos

que lo único que han hecho es luchar incluso hasta dando su vida

en este país y dicen que no tenemos competencia yo creo que en este parlamento nos hemos referido no pensaba que esa iba a ser la escusa traída por los pelos verdad de no aprobar esta iniciativa en cualquier caso tiene tres puntos la iniciativa

pero bueno yo creo que aquí ha habido declaraciones ha habido censuras a declaraciones de líderes políticos

pero también está la capacidad en este parlamento tenemos algunos de defender todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ustedes parece

pero en cualquier caso la ertzaintza es una institución vasca es una institución

del gobierno vasco y en un parlamento como el parlamento vasco debemos defender su buen nombre y no debemos permitir y debemos repudiar las palabras de aquel que intenta compararles con una banda de asesinos de aquel que quiere ir contra su dignidad contra la justicia y contra la verdad a que yo me refería antes claro que el señor otegi tiene libertad de expresión

en una democracia que él intentó acabar con ella claro que puede decir lo que quiera pero nosotros podemos reaccionar y es una vergüenza lo que dijo una vergüenza y nosotros aquí hoy debiéramos de declararlo así nosotros nunca hemos tenido ningún problema ninguno en decir que existen otras víctimas que deben d ser reconocidas y reparadas

que no se puede equiparar que no se pueden mezclar todas porque eso es un intento que durante mucho tiempo ha existido precisamente para disminuir

del terrorismo de eta precisamente se ha utilizado como coartada y como instrumento para eso por eso nosotros hoy aquí no entendemos la enmienda de los socialistas yo no entiendo las palabras del señor pastor en las que con las que puedo estar de acuerdo

lo que este grupo pide en este parlamento es algo bien sencillo y bien claro lo que no es tan claro señor pastor es por qué usted por qué ustedes no son capaces de apoyar esto

lo han presentado como iniciativa propia incluso hemos firmado conjuntamente una iniciativa en ese sentido en muchas ocasiones no sé como algo tan sencillo como que no se puede equiparar una banda de asesinos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

con la policía nacional con la guardia civil que hay que reconocer el trabajo que a favor de la libertad y los derechos de los vasco han hecho las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

de eso cómo no lo pueden ustedes compartir cómo quieren cómo además pueden decir que temas como este graves que declaraciones como esta que reconocimientos como estos que son absolutamente necesarios cuando son vilipendiados por declaraciones como esta que se tienen que hacer aquí en este parlamento

o a un instituto o a una ponencia es que no se pueden borrar cuarenta años de terrorismo no se pueden borrar cuarenta años de terrorismo en cuatro minutos lo que no puede ser es que ahora digamos por la paz un ave maría y aquí se hacen declaraciones tan sumamente graves

y no los podamos traer a esta cámara y no podamos pronunciarlos los representantes de todos los vascos que somos los que estamos aquí en el parlamento vasco y decir que es inadmisible

en sus propias carnes el terrorismo quien dio la vida

ahora sean acusados de asesinos por quienes durante mucho tiempo han estado en ese pasado de connivencia con los verdaderos asesinos creo

propuesta es algo bien sencilla que nuestra iniciativa en otro tiempo ustedes no solamente la hubieran votado sino que la hubieran firmado con nosotros
y créanme señor pastor amaitu llanos andrea voy acabando señora presidenta
no la pueden suscribir ahora y tampoco entiendo que el partido nacionalista vasco como decía no se pronuncie a favor de reconocer

de criticar declaraciones tan graves como las que el señor otegi

contra el terrorismo y especialmente el día de hoy parece un poco fuera de lugar

mirando al futuro como es un día de memoria y de recuerdo me van a permitir que lea un parrafito que pronunció hace unos meses

soy de la generación del sesenta y ocho estuve en parís y alemania y aprendí en toda mi euforia revolucionaria que el futuro no pasa por despreciar e ignorar el pasado

creo sinceramente que reconocer los hechos del pasado sin rencor es reconocer que nuestro presente ya es futuro y que eso debe ser la base para el entendimiento suscribo íntegramente a día de hoy esa reflexión

que estuvieron ayer es verdad que algunos dirigentes de euskal herria bildu estuvieron en el homenaje a fernando buesa y estuvieron a la tarde

y yo aprecio ese gesto pero ese gesto no puede quedarse en una cáscara vacía en una imagen en una foto hay que llenarla de contenido y esa tarea no es del resto de partidos que estamos en esta cámara es solo suya es de esa bancada y yo les pediría que se miren en el espejo en su propio espejo

y digan una palabra una frase muy sencilla matar estuvo mal y a partir de ahí
será mucho más fácil el camino del entendimiento eskerrik asko pastor jauna

ponencia víctimas de la violencia bi mila urteko azaroan burutu zena

agertzen dira bi zerrenda eusko jaurlaritzak proposatutakoak en el epígrafe once se puede leer

listado gobierno vasco hay una primera lista víctimas de eta hay una segunda lista víctimas de grupos militares armados sociales y autores desconocidos podría tener la tentación siguiendo lo que hizo basagoiti de leer

que aparece en este listado todos los asientos

el gobierno vasco sin embargo le remito a este informe

aparecen personas que estaban vivas antes de la actuación

de los grupos policiales o los grupos parapoliciales y que después de ese operativo

inboluzio bat ere kontsideratu daitekeena tenemos herramientas las estamos construyendo todavía creo que de forma muy imperfecta con las cuales desvelar

para sobre toda la verdad poder hacer un relato un relato que conozca un relato que reconozca y un relato que repare

asentándolo o construyéndolo o cimentándolo sobre falsedades sobre vacíos sobre casos sin investigar sobre casos sin clarificar reclamo el derecho de toda la víctima de toda víctima sea cual fuera su vulneración de derecho humano a tener el reconocimiento y reparación porque considero que cada caso uno cada circunstancia es irrepetible es un absoluto para aquella persona que la sufre sean como digo cuales sean las circunstancias

y demandamos también respeto a la libertad de expresión porque como hoy se ha dicho aquí hay algunas cosas que parece que no se pueden decir

depende que cosas se digan inmediatamente se van a poner en marcha iniciativas de criminalización se va a invocar la tipificación del enaltecimiento o tal vez en

que ahora se quieren traer demandamos en nuestra enmienda y así lo haremos en adelante

toda la verdad sobre la cual poder establecer un relato con apego a la verdad
y con apego a una lógica de nunca más

tiene su partido sobre todo el gobierno del estado un montón de herramientas disponibles para legislar en favor del reconocimiento

pero bueno me voy a referir más a las palabras que ha dirigido a los intervinientes

no creo que lo de hoy sea una cuestión de tibieza ni de falta de contenido creo que lo de hoy es una cuestión sensatez es una cuestión de que por

no es de recibo que las palabras de un representante político que ni siquiera

lleguen aquí para ser debatidas y encima para ser debatidas con un motivo muy concreto que es hacer un discurso de cara a su galería y la construcción de un relato que es el propio y no el compartido porque para la construcción de ese relato compartido me ha dicho antes que nos hemos dotado como la ponencia de memoria y convivencia en la que me reitero les invito a que participen porque no nos sobra nadie

presidente andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok señora llanos usted decía no entender por qué el pnv no puede posicionarse

apoyando su proposición no de ley yo creo que su problema señora llanos no es que no entiende su problema es que no atiende su problema es que no escucha su problema es que no quiere escuchar porque

es que la realidad la tozuda realidad estropee los prejuicios que usted tiene los juicios previos que le permiten mantener una estrategia política determinada porque nosotros yo hoy y el partido nacionalista

desde siempre y el lehendakari desde siempre se han posicionado en favor de la ertzaintza de los derechos humanos en favor de las libertades de todas las personas en este país y en contra de eta y lo hemos hecho siempre

y en contra de eta por lo tanto no es que usted no entienda el problema es que usted no atiende y así

para poder llegar a acordar señora llanos escucharse eta

le ha dado al señor otegi y a ustedes muchas lecciones por de pronto

asesinados por eta ante el silencio todavía hoy de

y eso es una tarea que tenemos pendiente y a la que tendremos que hacer frente también desde la ponencia

eraso hamabi erantzun vuestras agresiones tendrán respuesta lelopean

mundu mailan emakume bat erasotua izaten ari da cada quince segundos una mujer está siendo agredida

bi en este discurso sesenta mujeres han sido agredidas gaur egun ez daukagu

aldarrikapen feministak beste aldarrikapen guztiak estrukturatzeko tresna izan behar duela uste dugu somos conscientes que la mejora de las condiciones materiales

no acaba con la violencia machista sabemos que existen mecanismos de socialización poderosos como las instituciones educativas los medios de comunicación

y también una ideología de amor romántico que funciona como un rodillo de diferenciación y desigualdad

fomenta que entablen o permanezcan en relaciones insatisfactorias se sientan menos si no se tiene pareja u opten por la idea de que es mejor tener una

nos comprometiéramos de forma real y estructural en la lucha contra la igualdad

por causas personales y no por causas sociales lege honen prozesua izan dadila bide honetan urratsak emateko trena

a una violencia directa que es la forma más fácilmente reconocible de violencia daños físicos y emocionales de violencia estructural

en este sentido podemos hablar de precariedad económica que estuvimos hablando hace dos semanas de la feminización de la pobreza que hemos estado hablando hoy mismo en general se constituye como uno de los principales obstáculos

estableciéndose un claro caso de violencia estructural o tercero de una violencia cultural o simbólica que es aquella que justifica legitima y hace posible

consciente o inconscientemente como justas necesarias

semana trágica en la que hemos conocido nuevas víctimas de violencia de género sin duda el balance desde luego no llama para nada al optimismo

asunto que como digo desgraciadamente de actualidad a tenor de los últimos datos y de las últimas víctimas de la violencia de género violencia

hay que abrir una reflexión sobre el marco legal vigente una reflexión sobre la ley integral para la violencia de género dos mil cuatro y también una reflexión sobre todas las medidas que se arbitran desde las diferentes

públicas con una evaluación de las medidas que ya se han puesto en marcha con el fin de poder establecer nuevas medidas en el futuro nik gai honetan ere

dugula en este tema sí quería subrayar el acuerdo alcanzado

en el congreso de los diputados del partido popular y el partido socialista que ha sido posible lograr a través de la cual ha sido posible lograr un acuerdo

subcomisión en el congreso de los diputados con la participación de sesenta expertos que

zerbitzuak eta aipatu dudan bezala ebaluaketa creo que hay que incidir en distintos aspectos a la hora de abordar la violencia de género uno de ellos es sin duda las causas de la discriminación de género otra es las respuestas las medidas los servicios

incidiendo porque sin duda no es suficiente con lo que se está haciendo es la educación de los niños respecto a la igualdad

de sensibilización otro de los aspectos en los que sin duda hay que incidir también viendo las noticias dramáticas que estamos conociendo

es en una mayor protección y mayores medidas de seguridad en todo lo que tiene que ver con la formulación de las mujeres que se atreven a presentar

también una intervención específica con las mujeres que retiran una denuncia una vez interpuesta que son un quince por ciento y también con dar

ámbitos y también en una de las cuestiones en las que se va a hacer hincapié

en reparar el daño que sufren los menores que se quedan huérfanos etxebarrieta andreak aipatzen zuen ponentziaren

a la hora de abordar esta iniciativa planteada por eh bildu a nosotros nos parecía conveniente

hacer hincapié en dos cuestiones y sobre todo también teniendo en cuenta que habíamos tenido un pronunciamiento en esta cámara la de la legislatura anterior un acuerdo de fecha de veintisiete de noviembre de dos mil catorce

la eficacia y el alcance de los recursos y programas existentes y por otra parte también instar al gobierno vasco a la remisión de un proyecto de ley

por eso quiero decir que nos parece desde luego

reivindicaciones y propuestas planteadas por el partido popular han sido

se van a analizar los resultados de la evaluación continua de la atención a las mujeres víctimas que se hace en respuesta a la ley de igualdad

y por otra parte en línea también al debate que se sustanció hace dos semanas en

hace dos jueves hace quince días concretamente instar al ejecutivo a que en su calendario legislativo incluya un proyecto de ley para la remisión a esta cámara en la medida de lo posible lo antes posible

egun on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok en elkarrekin podemos damos la bienvenida a todas las iniciativas parlamentarias

debe ser uno de los problemas sociales prioritarios para este parlamento

en nuestro quehacer cotidiano en los últimos cuatro días cinco mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas el pasado fin de semana dos mujeres una adolescente de dieciséis años y una joven presentaron sendas denuncias por agresiones sexuales en tolosa y durango respectivamente una vez más el mensaje para las jóvenes las adolescentes las familias la sociedad en su conjunto es que disfrutar en libertad y sin miedo no es un derecho de las mujeres

una mujer sufre violencias machistas pero insistimos la calle la fiesta también son de las mujeres también son nuestras y desde elkarrekin podemos trabajamos y vamos a continuar trabajando para impulsar promover y apoyar todas la iniciativas que contribuyan a la prevención y erradicación

es obligación del gobierno de este gobierno del parlamento y del poder judicial la violencia es prevenible cada acto de violencia machista

debe interpelar a cada uno de vosotros a cada una de nosotras en nuestro rol y competencias sea cual sea la temática que nos ocupa

se ejerce en todos y cada uno de los espacios de nuestras vidas en todos y como decía esto es asunto no se nos olvide de todas y todos en esta casa en los últimos días hemos tenido la posibilidad de intercambiar analizar pensar y repensar

que proponía la creación de una ponencia para el estudio de las políticas actuales en relación con la violencia machista hoy llegamos al pleno con otra propuesta que poco bajo nuestro punto de vista tiene que ver pero que al igual que en el pleno

de febrero dibujan un escenario en el que constatamos que existe un consenso sobre la necesidad de revisar profundizar y actualizar las políticas y el marco normativo referido a violencias machistas sin embargo en cuanto a la actualización de paradigmas cómo y quién realizar el proceso nos cuesta y nos ha costado mucho

en género dos hitos en nuestra normativa dos instrumentos legales de enorme valor y avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres afortunadamente gracias al trabajo dedicado y comprometido de tantas profesionales instituciones organizaciones

y feministas cada vez conocemos más y mejor sobre el fenómeno de las violencias machistas sobre sus múltiples aristas y manifestaciones contamos con más datos con más experiencias de abordaje y normativa aquí y en otros países

el cual está en constante reflexión y construcción de conocimientos y propuestas y a la que debemos escuchar

nos negamos rotundamente a excluir este acumulado de riquísimos de años de experiencia y generación de conocimiento de cualquier proceso

cambios en base a procesos responsables y acuerdos amplios siempre repito siempre asegurando la participación activa y real de todos los agentes sociales políticos sindicales públicos y privados entendemos que es la única forma de avanzar en una normativa integral y que nos comprometa a toda la sociedad

de las herramientas existentes como es el segundo acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico y de violencia sexual

respuesta a la ley cuatro barra dos mil cinco con el fin de identificar los aspectos que requieren nuevas respuestas en el sistema de atención faltaría más

que hasta hoy se hayan estado haciendo y qué decir sobre la búsqueda de la formulación adecuada de una ley pues que desde elkarrekin podemos consideramos que es urgente y necesario

imaginamos el esfuerzo del gobierno por incorporar metodologías que permitan la participación de diferentes sectores contribuyendo a la sensibilización social

sin embargo y aun votando a favor tenemos serias dudas sobre los paradigmas el cómo y con quién pretenden llevar estos procesos

que si bien se ajustan a la normativa vigente son claramente reducidas insuficientes para dar cuenta de la complejidad del fenómeno y de las múltiples aristas

saltos cualitativos en sus normativas de carácter integral tanto en sus objetivos en las medidas propuestas en la participación así como en la comprensión y descripción de todas las formas de violencia

nos están planteando que sería solamente la comisión de seguimiento la cual tiene establecido un mínimo de dos reuniones ordinarias por año

de la cual en la página de emakunde no disponemos del informe de seguimiento y evaluación anual desde dos mil nueve igual yo no he sabido encontrar más informes que puede ser pero creo que no está recogido

el único espacio adecuado para promover una metodología participativa con el objetivo de evaluar políticas

y si hablamos del con quien en este caso no queremos una participación para la sensibilización como se propone en el tercer punto de la enmienda desde elkarrekin podemos queremos una participación de mujeres

de redes de sindicatos con reconocidas trayectorias con voz y con voto por supuesto

y formular una ley la comisión de seguimiento que se menciona en el acuerdo llegado y que hoy debatimos aquí

únicamente por autoridades del poder judicial fiscalía gobierno vasco diputaciones eudel

y consejo médico vasco no se vislumbra como el espacio de trabajo que necesitamos

profesionales de la intervención social o expertas en la materia

creemos que este espacio es insuficiente sí es necesario pero no suficiente por todo esto y aun votando a favor vamos a continuar trabajando para que entren en este parlamento con voz y voto todos los agentes que tienen tanto que decir sobre violencias machistas

sobre cómo atender sobre cómo proteger sobre como reparar porque son imprescindibles para elaborar una normativa que responda a los desafíos de la realidad

muchas gracias presidenta señorías en este punto del pleno debatimos una iniciativa del grupo eh bildu relativa a la eliminación de la violencia machista en nuestra sociedad

llevamos dieciséis víctimas este año seis víctimas en los últimos cuatro días llevamos en dos meses un veinticinco por ciento más de víctimas con respecto al total del año pasado creo firmemente sí hay una materia en la que todos los partidos estamos de acuerdo

algún día la eliminación en nuestra sociedad de la violencia de genero

en cuestión la voluntad de todos los partidos políticos de esta cámara ni del gobierno vasco para la lucha contra esta lacra social eso es una realidad es por ello por lo que también mi grupo parlamentario los socialistas vascos consideramos que si hay algo en lo que debemos de ser capaces todos los grupos políticos

el mayor consenso posible para sacar iniciativas en este parlamento adelante que vayan en esta dirección y por eso me alegro enormemente también

entre todos los grupos políticos para que hoy se apruebe esta enmienda transaccional y aunque

ha sido firmada por los grupos nacionalista vascos socialistas vascos y eh bildu y podemos el grupo popular va a votar a favor aunque no la ha firmado pero todos en conjunto hemos trabajado en la redacción de la enmienda

en ella se recoge instar al parlamento vasco a realizar un proceso de trabajo que posibilite el marco de la comisión de seguimiento del segundo acuerdo

víctimas de violencia en el ámbito doméstico y la violencia sexual una actualización de dicho acuerdo que incluya entre otros la adecuación de protocolos cuestión que también se pedía aunque con otra redacción en la iniciativa original en segundo lugar analizar los resultados de esa evaluación continua

además de los que resulten del contraste de los entandares internacionales de calidad en la atención a las víctimas de la violencia contra las mujeres

de identificar los aspectos que requieren nuevas respuestas en el sistema de atención y en tercer lugar a que en su calendario

la ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres y que además le dé prioridad

que se utilicen en la misma metodologías que permitan la participación de diferentes sectores contribuyendo la sensibilización social sobre dicha problemática

de violencia contra las mujeres es un compromiso que figura en el acuerdo de gobierno firmado entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista

para los dos grupos del gobierno esta materia y si el gobierno elabora el borrador de esta ley en breve podemos tener en esta cámara

se solicitarían las comparecencias que se consideraran necesarias y crearía una ponencia para el debate en las enmiendas es por ello que no veíamos

en estos momentos de esta ponencia esta iniciativa idéntica se presentó en el pleno del veintisiete de noviembre de dos mil catorce los grupos parlamentarios

no estábamos de acuerdo con la presentación de esta iniciativa del grupo eh bildu y no creíamos necesaria la creación de la ponencia entonces

de los recursos y programas existentes en la comunidad autónoma en torno a la violencia contra las mujeres así como a realizar un análisis

y proponer medidas adecuadas para responder a las necesidades detectadas análisis importante antes de abordar la elaboración de esta ley aquí también se instaba desde este parlamento vasco a intensificar la coordinación entre los diferentes departamentos en materia de igualdad y contra la violencia de las mujeres y así como la colaboración

que trabajan en este campo se ha seguido trabajando en ello entonces no consideramos necesario la creación de la ponencia porque como bien se ha dicho ya hubo una ponencia en la octavo legislatura y ahora tampoco

contra las mujeres y la violencia doméstica más conocido como convenio

y que ha entrado en vigor en españa el uno de agosto

y esta violencia se recoge como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación considerando responsable a los estados

este convenio es el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra las mujeres y violencia doméstica siendo el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de derechos humanos

a la violencia hacia la mujer los fundamentos de este convenio son

y proteger a las víctimas sensibilizar a la sociedad para que cambien las actitudes y rompan con la cultura de tolerancia y negación que perpetua la desigualdad de género y la violencia que la causa destacar la importancia de la actuación coordinada

pertinentes y la sociedad civil y la importancia de la recogida de datos estadísticos y de investigación sobre todas las formas de violencia contra la mujer coincide con los diez años de vigencia en españa de la ley

contra la violencia de género ley aprobada por un gobierno socialista y pionera que marcó un antes y un después

en nuestro país pero en la actualidad aunque hemos dado pasos importantes hay datos preocupantes nos preocupa la reducción del número de denuncias

del proceso judicial y el crecimiento de las resoluciones judiciales de archivo de denuncias y de denegación de órdenes de protección queda mucho por hacer todavía esta realidad lo pone de manifiesto y quiero destacar un punto dentro del convenio de estambul que señala que la igualdad legal y real es el elemento clave de la prevención de la violencia contra la mujer y vinculan desigualdad y violencia lo cual es importante tener en cuenta dado que en españa en los últimos años

recortes considerables en los presupuestos tanto en políticas de igualdad en torno a un veintitrés por ciento

en torno a un cuarenta y nueve por ciento en las comunidades autónomas en su conjunto se ha reducido el presupuesto destinado a las mismas en torno a un treinta y dos por ciento solo el país vasco y andalucía han mantenido un presupuesto sin recortes y eso hay que ponerlo en valor tenemos que concienciarnos que la realidad de iure y de facto de la igualdad entre mujeres y hombres

clave en la prevención de la violencia contra las mujeres y tenemos que seguir trabajando para no ir en materia de igualdad para atrás y no para adelante

llegado hoy y que haya consenso en esta materia entre todos los grupos parlamentarios de la cámara tenemos por delante un reto

contra las mujeres en nuestra comunidad autónoma que tenga en cuenta las novedades que se han producido en los últimos años y los fundamentos del convenio de estambul

con el mayor consenso posible para conseguir cuanto antes una ley que mejore los resultados obtenidos en materia de violencia contra las mujeres hemos hecho un esfuerzo de acercamiento todos los grupos políticos en esta enmienda transaccional y hemos conseguido una buena enmienda transaccional

son importantes también y fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género y me alegro de que la transaccional que hoy vamos a aprobar mejore

y como decía en esta última reunión se planteó la necesidad de elaborar un tercer acuerdo interinstitucional por tanto entre los retos y compromisos para

acuerdo algo que supone un proyecto de gran magnitud y contraste imposible abordar en un corto plazo pero

que recogiera nuevas prioridades pautas de actuación y enfoque

para que se incorporaran enfoques y obligaciones derivadas de la normativa internacional

vigentes actualmente y actualizar de este modo principios generales y protocolos siendo además preciso dar visibilidad a hijas e hijos víctimas de violencia vamos que un trabajo de reflexión que coordinado desde emakunde

podrá dar voz mediante un proceso participativo no solo a las instituciones implicadas sino que también a los expertos y expertas en la materia y al movimiento asociativo tal como se hizo con la revisión de la ley de igualdad de dos mil cinco la pasada legislatura además emakunde se compromete a dar cuenta al parlamento de las labores que vaya realizando en este tema algo que por otra parte

de los programas y acciones que se ponen en marcha desde su dirección

un hueco lo más rápido posible para dar respuesta a las dudas y cuestiones que desde los grupos parlamentarios

agradecer siempre esa labor por tanto volviendo a lo recogido en el acuerdo lo interesante de este proceso es que este análisis

por lo que entendemos que es una labor de profunda reflexión y muy necesaria de ahí

todo este proceso ya estaba en marcha por lo que de verdad le agradezco a la señora

de reflexionar y de poder darle una vuelta de tuerca porque a fin de cuentas efectivamente no es el modo sino

también recoge la transaccional en su punto segundo que se analizarán los resultados de las evaluaciones continuas de la atención a mujeres víctimas que se hace en respuesta de la ley bueno es un punto muy extenso que la señora arana también

nahiko nuke arana andreak esan du bueno si no lo han hecho hasta ahora que lo hagan lo han hecho

no es risa es ironía pero por lo obvio de lo que se plantea en ese punto de verdad

está integrada con voz y voto únicamente por ciertas autoridades no representa todo que es importante sí pero no es lo único importante

sinceramente y aun votando a favor de lo que nos alerta lo que nos

es la insistencia por parte de las fuerzas políticas que conforman el gobierno de no querer

nos choca y mucho que no quieran crear un espacio de trabajo debate escucha y reflexión

para que las jóvenes que lo sufren y lo sienten día a día para que las juezas abogadas personas profesionales de la salud

pasen por este parlamento a contarnos sus puntos de vista sus inquietudes sus conocimientos no entiendo

y que no se quiera debatir aquí sobre por ejemplo la terminología que es muy importante no es lo mismo violencia de género que hablar de violencias machistas en plural y saben por qué se ha empezado a utilizar esta terminología se lo explico

y también porque es una reivindicación del movimiento feminista que nos lo están reclamando

que podamos hacer una ley que tenga el consenso de toda la ciudadanía también es necesario debatir sobre qué tiene que recoger esta ley y en base a qué debe realizarse insisto es importante abrir el debate a la sociedad a través de una ponencia o una comisión especial y ustedes no sabemos muy bien por qué no quieren oír hablar de eso en definitiva se hace necesario un consenso social y político y para ello es necesario que esta ley sea participativa y que por aquí por este parlamento pasen todos los agentes sociales políticos

públicos y privados y sobre todo es necesario contar con nosotras las mujeres las que sufrimos las violencias machistas fruto de este sistema heteropatriarcal

y en ocasiones en demasiadas nos mata muchas gracias eskerrik asko arana

brevemente bueno señora etxebarrieta yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante la enmienda transaccional

iniciativa original he explicado las razones por las que no veía la ponencia y ahora mismo como usted bien ha dicho evidentemente la situación es diferente también estamos a las puertas de la

contra la mujer dentro de nuestra comunidad autónoma y además tenemos todo el trabajo recogido y que se va a realizar en el acuerdo interinstitucional y además van a poder participar

interrelacionados con el trabajo día a día en la lucha de la violencia contra las mujeres y por tanto yo creo que los pasos que hay que dar

a la hora de llegar a la finalización y a la conclusión

enmienda y yo creo que además en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres tenemos que

toda la sociedad tenemos que estar ahí tanto las mujeres como los hombres defendiendo los planteamientos de igualdad

porque como bien he dicho esa desigualdad es la primera

directamente porque está interrelacionada con la violencia contra las mujeres sin más

agradecer el esfuerzo que hemos realizado todos y la enmienda transaccional a la que hemos llegado porque es positiva nada más y muchas gracias eskerrik asko

ematea de mi boca no habrá oído que yo rechazo de plano cualquier creación de una comisión y una ponencia no lo he dicho aquí desde luego en ningún momento lo que he dicho es que estábamos

es lo que le expliqué a la señora etxebarrieta y no sé si usted lo ha entendido bien y es que ese trabajo que la señora etxebarrieta pretendía que se hiciera dentro de la ponencia

porque está adoptado el catorce de junio del dos mil dieciséis hemos tenido

lo coordine y el compromiso de emakunde que está recogido en esta propia transaccional de que lo hará además siguiendo un proceso participativo donde tendrán cabida

eso por un lado eso ese trabajo ese diagnóstico ese análisis me servirá de base para la elaboración de la ley

sindicales que usted ha comentado todos los agentes implicados en el tema

a hacer las aportaciones que crean convenientes a dar su opinión vendrán todos aquellos

esté usted tranquila no hay problema pero desde luego de mi boca no ha oído en este estrado ni desde luego en esta sala decir que de plano rechazamos que acudan

duplicar los esfuerzos y el trabajo porque lo que está haciendo el acuerdo y lo que se puede hacer dentro del marco del acuerdo lo que no vamos a hacer es crear una ponencia para que haga lo mismo cuando sobre todo

a trabajar se va a desarrollar mucho más allá contemplando todo aquello que los grupos queríamos que es que haya más participación

aldetzeko señorías

popular que tiene referencia al sector de la hostelería

de una entidad y relevancia específica en la acción del gobierno vasco y que entendemos desde el grupo popular que debe tener su reflejo y visibilidad

restauración y similares en la nueva ley de turismo aprobada en julio de dos mil dieciséis quedaron excluidas como actividad turística por lo que su calificación que estaba recogida en la anterior ley

de alguna manera anulada esta excusión del sector de la hostelería de la actividad turística deja

y desde el grupo popular tenemos muy claro la importantísima relevancia que el sector de la hostelería tiene en la comunidad autónoma vasca

nuestros pueblos y ciudades formando parte del tejido social de los núcleos urbanos y que además de la relevante aportación que representa para el pib turístico contribuye a poner en valor nuestros productos locales

por todo esto entendíamos desde el grupo popular que era necesario otorgar un nuevo estatus al sector de la hostelería del país vasco hacer visible la hostelería en la estructura del gobierno

proponíamos que el gobierno vasco crease dentro del departamento de turismo comercio y consumo una viceconsejería de turismo

y trasladada esta petición al gobierno parece ser que una viceconsejería en esos términos implicaría ampliar una dirección de hostelería y esto no era

amplíe su ámbito y sea dirección de turismo y hostelería

cumplidos o reflejados en esta dirección si bien no son una actividad turística sí están dentro de la acción

como decía con esta iniciativa hacemos visible la hostelería en la estructura del gobierno

conscientes de que hay mucho por hacer para propiciar que

juegue en la liga en primera que sea un sector potente

y decía que el dos mil dieciséis es el año de recuperación de la hostelería la cifra del negocio de la hostelería ha crecido con fuerza en dos mil dieciséis con una media de un seis coma ocho por ciento sobre el año dos mil quince según los datos del instituto nacional de estadística

un uno coma siete puntos más que el crecimiento que se dio en dos mil quince que fue del cinco coma uno por ciento si nos fijamos por comunidades autónomas tenemos

con un catorce coma cinco por ciento y un diez coma dos por ciento respectivamente y comparado con el año anterior

avances se dieron en baleares con un cero coma cinco por ciento

en el crecimiento de la cifra de negocio de la hostelería no tenemos un buen dato no avanzamos de una manera satisfactoria tenemos

mucha desventaja con otras comunidades autónomas como la de castilla y león por ejemplo y por lo tanto tenemos un trabajo ímprobo para potenciar el sector de la hostelería
en la comunidad autónoma vasca nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz

egun on guztioi en primer lugar no puedo resistir a la tentación de dar la bienvenida al partido popular al debate sobre el nuevo estatus

a ver si también con el tiempo nos unimos a ese otro debate uste dugu hemen ostalaritzaz hitz egingo dugula eta ikusita erdibidekoa badagoela akordioetara

ostalaritza eta turismoa y creemos que evidentemente por una cuestión práctica

de las materias por una cuestión conceptual la hostelería tiene mucha más relación con el comercio que con el turismo de hecho en la cuenta satélite del turismo se informa de que apenas un dieciséis el dato es un poco antiguo probablemente el

un veinte por ciento del gasto de la hostelería o de la hostelería está relacionada con el sector turístico quedándonos más de un ochenta por ciento de actividades hosteleras fuera

es evidente que aunque hay una importante conexión de la hostelería con el turismo no toda la hostelería es turismo creemos que tiene más regulación y más relación con el comercio y nosotros tampoco pediríamos la creación de una dirección específica porque no queremos fomentar la inflación

y a tenor de una lectura rápida de los presupuestos ya se encargan ellos mismos de fomentar esa inflación porque han multiplicado el número de altos cargos no queríamos inflar el organigrama pero sí queríamos que la gente del sector de la hostelería tuviera clara

en el gobierno vasco a la que dirigirse y desde la cual se van a atender a sus peticiones decía que para nosotros hubiera sido mucho mejor que esa ventanilla fuera compartida con el ámbito

la hostelería y el comercio gemelos sí podríamos decir que son mellizos porque se parecen bastante desde diferentes aspectos desde un punto de vista urbanístico entendemos que la actividad hostelera y la actividad comercial se desarrollan a lo largo de un continuo de un continuo físico

urbana de nuestros pueblos y ciudades es la secuencia es viviendas bares tiendas tiendas bares viviendas según las zonas pero es lo que conforma

la trama de las calles por las que circulamos y evidentemente hay una continuidad hay una contigüidad y creemos que hay un continuum que merece la pena que desde esa perspectiva urbanística

tanto la hostelería como el comercio son aspectos que contribuyen a la socialización al ocio incluso a la seguridad la iluminación de las ciudades en fin desde un punto de vista físico geográfico hay una gran afinidad entre la hostelería y el comercio

y de gestión de este tipo de establecimientos entendemos que ambos también comparten una estructura muy similar

por el eustat once mil cuatrocientos tienen menos de cuatro trabajadores es decir estamos hablando

que tienen una idéntica distribución en cuanto a tamaño

en el sector del comercio también hay un tercio de empleados en el ámbito de la hostelería que son autónomos

entre el comercio y la hostelería las necesidades y las reclamaciones de ambos sectores son también similares los problemas son similares

la continuidad familiar la necesidad de mejorar la preparación de los gestores de los negocios la formación entendemos que son muchas más

a la hostelería con el comercio y creemos que conceptualmente es mucho mejor que se llevaran

en una misma dirección pero en el fondo lo importante y por eso tampoco nos vamos a oponer

lo importante es que la hostelería va a tener un reconocimiento es una actividad de suficiente entidad e identidad como para ser reconocida no pensamos

o de hermana pequeña de otros sectores de la economía tiene una entidad propia y aunque como decía antes de cara a la economía de recursos no proponíamos la creación de una consejería ni

específica sí entenderíamos que la gestión sería mucho más fácil

la dirección de comercio por tanto sea en un ámbito u otro sea dentro de un modelo organizativo u otro renovamos nuestro compromiso a apoyar la actividad de la hostelería por su importancia económica

puestos de trabajo que genera por su importancia social y por su importancia cultural y seguiremos trabajando por un modelo de calidad y un modelo propio en la hostelería eskerrik asko

sí gracias presidenta consejero buenas tardes hablar a estas horas de la hostelería

sí me gustaría indicar que la ley de turismo de mil novecientos noventa y cuatro regulaba hasta agosto del año pasado la actividad de las empresas operantes en el sector turístico entre ellas estaba este sector de la hostelería y esa ley también regulaba el papel de las administraciones públicas

los representantes del sector de la hostelería nos mostraron su inquietud por las consecuencias que la derogación

porque perdían absolutamente su marco regulatorio que estaba basado en cuatro artículos fundamentalmente y ello les ocasionaba ya un problema de interlocución y de relaciones administración pública el consejero de turismo comercio y consumo hace casi un mes expuso en este parlamento en su comparecencia sobre las líneas

la consideración de la hostelería como un sector de atención importante y prioritario también por parte de su departamento porque la hostelería es uno de esos elementos que caracterizan la oferta turística de euskadi también y por eso hay un compromiso de este consejero para promover e impulsar las acciones de innovación y modernización

y con el ánimo de restablecer la relación administrativa entre el departamento de turismo comercio y consumo del gobierno vasco algo en lo que el propio sector de hostelería nos había insistido ya desde el mes

hemos llegado por fin a un acuerdo para dar respuesta a aquella solicitud y algo más que una solicitud a aquella inquietud porque la hostelería como actividad turística representa el dieciséis coma siete por ciento de la producción global

de todo el sector en euskadi emplea a más de cuarenta y nueve mil personas y aporta algo más del cuatro coma cinco por ciento del producto interior bruto

euskadi como la energía la sanidad la educación la vivienda la agricultura la pesca

o incluso el propio turismo tienen todos esos sectores una interlocución

legalmente además por la administración de euskadi y esto no ocurre ya desde agosto del año dos mil dieciséis desde agosto del año pasado con el caso del sector de la hostelería por eso desde la entrada en vigor de la actual ley resultaba entonces y resulta todavía necesario articular de forma definitiva una relación

una relación como digo estable y definitiva que abandonando la dependencia de un sector que estaba vinculado a la voluntad del gobierno de turno pudiese tener ya ese marco regulatorio

y donde buscar solución a sus problemas por eso nos parecía importante

sustancial el acuerdo al que hemos podido llegar en este caso con la proponente de la iniciativa original un acuerdo en el que se insta al gobierno vasco en lo que se refiere al departamento de turismo comercio y consumo a modificar la denominación de la actual dirección de turismo

de dirección de turismo y hostelería desde la que se establecerán aquellas acciones y medidas necesarias para el desarrollo óptimo del sector de hostelería de euskadi y decía quien me antecedía en esta tribuna en el uso de la palabra

más apropiado la vinculación con el comercio bueno tenemos una nueva ley de turismo desde julio del año dos mil dieciséis que se puso en vigor en el mes de agosto

profuso yo creo que eran más de doce reglamentos los que había que iniciar por lo tanto vamos a encontrar en esta dirección de turismo y hostelería

aquellas cuestiones que en la hostelería todavía están pendientes porque habrá que hacer alguna modificación quedan asuntos pendientes como la inspección de los establecimientos de hostelería

es que no se sabe cómo articular esas inspecciones de los establecimientos

esa nueva ley de turismo nos va a posibilitar el hecho de engarzar las necesidades del propio sector cosa que es además de importante necesaria para el mismo

el beneplácito y la satisfacción del propio sector que nos ha hecho llegar en fin pues cómo están absolutamente de acuerdo y contentos en que les hayamos

y que por lo tanto nos agradecen y agradecen a esta cámara el esfuerzo y la aprobación de esta iniciativa que hoy

por lo tanto creo que es hora y momento de felicitarse era un problema encajar este asunto con la denominación en la propia viceconsejería como se ha comentado eso suponía generar una nueva dirección lo cual conllevaba a su vez gastos en

en medios materiales cosa que se veía incluso hasta quizás algo excesivo por lo que pueda representar el sector de la hostelería en el sector en conjunto económico de euskadi por lo tanto creo que hemos encontrado una buena ubicación a satisfacción además del propio sector que estaba

muchos meses y que por lo tanto hemos sabido dar respuesta a una necesidad que era más que evidente nada más y muchas gracias

aisialdirako sektore oso inportante bat da en relación al turismo o más diría yo a la cadena de valor de la industria del turismo y también a la cadena de valor de la industria de la gastronomía también se ha dicho y de manera correcta que no todo

de la horeca tiene orientada su actividad hacia estos dos sectores que acabo de citar

la verdad es que tienen una participación absolutamente clave y muy importante son uno de los aspectos de esa cadena de valor que

clave entre otras cosas porque cada vez somos más conscientes de la importancia de la gastronomía tanto a nivel social como económico y hoy la gastronomía en cuyo sector o cadena de valor insisto tiene una participación muy importante la hostelería

placer calidad salud sostenibilidad es ya incluso una actitud ante la propia alimentación

más de un tercio del gasto de un turista se dedica a la alimentación viajamos para conocer otros países otras culturas para conocer sus gentes

pero también y cada vez en mayor medida atraídos por la gastronomía la gastronomía por tanto está presente en nuestras decisiones cuando viajamos el peso de la gastronomía y por tanto insisto de los establecimientos del sector horeca a la hora de

es cada vez más importante está demostrado que cuando viajamos tenemos en cuenta la gastronomía para decidir a dónde ir y qué visitar la gastronomía además del alojamiento es un atractivo más

los diferentes turistas según diferentes estudios en euskadi más del veinte por ciento de los turistas que nos visitan dicen que lo hacen

gastronómico yo creo que aquí hay dos factores que han influido mucho en

la gastronomía y también insisto el propio sector de la hostelería yo creo que merece la pena resaltar por un lado está la marca cocina vasca porque la cocina tanto la de antes como la de ahora es esa que se apoya en sus raíces pero sin perder la vista en la innovación y

la labor de los cocineros de dar visibilidad a la cocina de un país es tremendamente importante y forman parte incluso claramente

en este sentido nosotros pensamos que es necesario apoyar

para que promuevan y divulguen su cocina el segundo aspecto por el cual

gastronomía y también de la hostelería va en alza

en mi opinión debido a la diversidad de oferta con la que contamos los turistas en euskadi pueden optar por una propuesta tan popular cercana y socialmente tan valorada como pueden ser los pintxos o por un bar restaurante tradicional con productos de alta calidad que son sanos y además

también tienen la opción de vivir experiencias únicas en auténticos templos gastronómicos reconocidos a nivel mundial por su innovación

citar como mínimo a nuestros cocineros y restaurantes tres estrella michelín como pedro subijana con el akelarre

y cómo no al gran maestro de todos los maestros en mi opinión que es juan mari arzak y su hija elena que lleva la friolera

años y se dice pronto veintiocho años manteniendo el estatus de tres estrellas michelín yo no sé si nos damos cuenta realmente del significado que tiene todo esto efectivamente tras la aprobación de la ley de turismo había que

paralelamente a la aprobación de la propia ley ya se negoció con el sector la necesidad en efecto de reubicar institucionalmente el sector de la hostelería y sus correspondientes planes sectoriales de ayuda a su mejora competitiva

creo que es básicamente un acuerdo satisfactorio donde lo importante y creo que aquí también se ha subrayado son

los planes sectoriales y medidas que podamos implementar y que pueda implementar el propio gobierno vasco para el desarrollo óptimo del sector de la hostelería en euskadi y su mejora competitiva es lo importante ordu

buenas tardes a todos como ustedes bien saben la ley de turismo se aprobó en el último pleno de la pasada legislatura

fue en el transcurso de un pleno extraordinario donde fue aprobada sin ningún voto en contra

y de upyd algunas de las parlamentarias que están participando en el debate

pnv y el partido popular fueron críticas con los tiempos y las prisas con las que se sacó adelante esta norma hace ya algunos meses y con el objetivo de que fuera aprobada

convocara elecciones anticipadas y disolviera la cámara vasca se catalogó esta ley como chapucera y trasnochada y se señaló que contenía lagunas importantes de hecho

manifestaron su preocupación porque la regulación que se pretendía dependía de un desarrollo reglamentario posterior bastante profuso la ley busca regular

desde las tradicionales hasta las más emergentes como los apartamentos turísticos desde elkarrekin podemos

no contemple medidas para evitar masificaciones en los pueblos costeros y capitales y para que la diversificación de actividades turísticas sea una realidad en el futuro y repercuta de forma positiva en la economía de los múltiples municipios de euskadi más allá de gasteiz

una ley hecha a toda prisa con lagunas reglamentarias que están saliendo posteriormente y que nos lleva a estar hoy debatiendo esta pnl que nos ha presentado la señora lópez de ocariz no se hicieron bien en su momento y hoy nos encontramos con una ley de turismo insuficiente desde elkarrekin podemos apostamos por una ley de turismo que apueste

y de calidad en nuestro territorio en la actualidad el turismo es uno de los sectores más importantes y en plena expansión de la economía mundial siendo un sector cada vez más importante en la nuestra los resultados de la actividad turística en euskadi así lo confirman también en lo referente al empleo generado ya que este sector se estima que dependen más de cien mil personas

no obstante que se trata en muchas ocasiones de un empleo precario desde elkarrekin podemos estamos a favor del turismo pero estamos en contra de que sea la única apuesta en detrimento de otros sectores y actividades sin embargo

que el turismo tiene otras caras sin coordinación y planificación la demanda de servicios públicos puede exceder su capacidad con resultados negativos tanto para la población residente como para los turistas el impacto de la actividad turística se deja sentir de manera profunda sobre el entorno

y la sostenibilidad medioambiental el turismo sostenible

con el bajo impacto sobre el medio ambiente y cultura local al tiempo que contribuye a generar ingresos y empleos para la población el apellido sostenible

la sensibilidad hacia la naturaleza la cultura y las formas de vida de la población de los lugares donde se viaja asimismo el desarrollo sostenible del turismo

de todos los agentes relacionados con el sector para lo que se han de tener en cuenta criterios desde la perspectiva del triple balance económico medioambiental y social de aquellos polvos estos lodos una ley aprobada a toda prisa

los apartamentos turísticos que entendemos que es importante pero no es lo único que tenía que abordarse creemos que si el proceso de elaboración hubiera sido más participativo y se hubiera contado con los diversos agentes del sector podría haber salido mejor

del gobierno vasco en esta legislatura y han sacado las áreas de turismo comercio y consumo del departamento de desarrollo económico en el que estaba incluido en la anterior legislatura

que se ha llevado a cabo como la colocación de empleo y de trabajo en diferentes departamentos esta decisión de dotar de entidad propia al turismo al comercio y al consumo considerándolos un departamento en sí mismo nos parece una decisión acertada y la valoramos de forma positiva

la pnl que nos ocupa hoy y que presenta el pp propone otorgar a la hostelería un nuevo estatus

que se deshace de consumo y de comercio entendemos que para ustedes este asunto no sea relevante

la hostelería es un sector importante sí en euskadi qué duda cabe pero la labor institucional debe permanecer coordinada con comercio y con consumo los comercios y la hostelería son una parte muy importante de la vida de nuestras ciudades por eso creemos que deben ser los municipios

quienes tengan capacidad de comunicación con este sector son los municipios los que en nuestra opinión tienen una posición privilegiada desde la participación ciudadana

más acertados de las diferentes necesidades en materias de consumo comercio y hostelería queremos unas instituciones más cercanas y participativas en constante interlocución directa con las personas asociaciones que habitan y se organizan en cada barrio son ellas las que tienen que dictaminar las políticas que hacemos en esta cámara y en otras instituciones y eso no se nos tiene que olvidar

en la pasada comparecencia del señor retortillo como nuevo consejero de turismo comercio y consumo ya dejamos claro

no pueden girar exclusivamente en torno a la hostelería y a la gastronomía para nosotras los consumidores y consumidoras formamos uno de los grupos de interés

determina y configura el mundo en el que vivimos manifestamos nuestra intención de que es necesario también cambiar el modelo de consumo y generar y promover un consumo más responsable

además de promover y promocionar el pequeño comercio por todo esto

que integra la hostelería en el nombre del departamento viene a pedir lo mismo que lo propuesto por la enmienda

y nosotros vamos a abstenernos ustedes saben mejor que yo que la ley de turismo a la que hacen referencia

tiene muchas lagunas reglamentarias debido a la necesidad de lo acelerado

no podíamos estar en contra de reforzar y reformular el actual marco de relaciones

va en el adn de elkarrekin podemos el cambio de sistema para lograr convertir la institución en un espacio abierto y participativo pero no solo como vienen haciendo con las asociaciones de hostelería de euskadi también con todas aquellas pequeñas organizaciones y personas autónomas

sin importar si es martes o domingo con todos y ustedes no están creando esos cauces por todo ello
tendremos que abstenernos muchas gracias eskerrik asko garcía andrea

al gobierno señor consejero gracias a los grupos que apoyan al gobierno por haber podido llegar a este acuerdo que es

en el nombre de la estructura del departamento del gobierno por lo tanto para ellos bueno pues es un estatus que no han tenido nunca y están

en qué dirección quedarse es verdad que tienen el corazón partido y así me lo han dicho tienen relación con el comercio siempre han estado más próximos en lo que es estructura de gobierno al turismo lo han elegido ellos

yo les respeto plenamente claro que también conforman parte de la vida social de los núcleos urbanos lo he dicho si un ayuntamiento quiere testar el sentir

se aproxima a quién al comercio y a la hostelería y por eso participan en los foros de los ayuntamientos claro que sí y ellos están orgullosos de participar ahí y nos decía el señor casanova

que esta iniciativa hoy mire hay veces que

no participamos o no apoyamos la ley de turismo

no era que la hostelería figurase en el nombre de la estructura queríamos que estuviese recogida

no fue posible ustedes apoyaron la ley de turismo y no nos lo admitieron pero ha sido bueno porque hoy estamos consiguiendo que la hostelería esté en la estructura del gobierno y por lo tanto

garcía la ley de turismo se aprobó después de desarrollar esa interlocución intensa con todos los agentes del sector

con su acuerdo expreso y con su petición expresa de que efectivamente esa ley se aprobara lo antes posible este grupo como creo que entenderá perfectamente pues las urgencias del gobierno del señor urkullu pues le da la importancia

de todo un sector económico que veía peligrar cientos o miles de puestos de trabajo por un agujero legislativo

y esa es la razón por la que nosotros aprobamos la ley a pesar de que efectivamente se nos obligó a acortar los plazos pero eso no fue óbice para que la ley como

de forma unánime por el sector y que además la ley fuera buena y el debate que estamos teniendo hoy aquí no tiene nada que ver con los ritmos de tramitación de la ley porque la decisión de regular o no regular la hostelería en esa ley no fue una decisión que se tomara porque había prisa y no se podía meter tres o cinco artículos más

y aquí los que han hecho el giro copernicano son otros aquí

que el turismo no era el marco adecuado para regular los problemas de la hostelería porque tenía una dimensión y unas características propias y fue por una decisión

artículos por eso me resulta extraño ahora que se pretenda volver a reivindicar a través del desarrollo reglamentario la necesidad de tratar la hostelería desde este ámbito a mí es que me daría igual en principio

o desde el ámbito del comercio la cuestión es que tan solo el dieciséis por ciento de la hostelería tiene relación con el comercio y hay muchos bares y negocios de hostelería en este país que jamás en la vida van a ver un turista a no ser que se le estropee el gps al turista y esos bares y negocios

sería mucho más adecuado desde el ámbito del comercio pero en todo caso

que es que precisamente sean galgos o podencos al final que no nos pille la discusión

una ventanilla a la que se puedan dirigir las personas de ese sector

que como todos sabemos porque tenemos interlocución con ellos no son necesidades de más regulación si no nos están pidiendo leyes

si vienen aquí los responsables de hostelería y nos dicen que tienen que tener entre quince y veinte letreritos en cada bar porque

no es de regulación es de apoyo y ellos y ellas además expresamente hacen una comparación sobre el tipo de apoyo que desean de apoyo que desean es el apoyo que tiene el sector del comercio y por eso también en ese sentido

pero ya le digo no es un casus belli ni una razón para decir que el acuerdo de hoy sea extremadamente malo pues bueno al fin y al cabo no es todo lo bueno que podía ser pero atiende a la cuestión principal que es que exista una referencia para que el sector de la hostelería pueda ser atendido

en el debate de la ley de turismo fue una decisión premeditada y una decisión del carácter analítico en que el turismo quedara al margen pero ya digo

y más apoyo que es lo que nos demandan eskerrik asko casanova jauna

bertatik sí gracias presidenta desde el escaño si me lo permite y brevemente

quedaran dudas en aras a la intervención que ha tenido la representante de elkarrekin podemos el partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra en esta cámara lo que dio a la ley de turismo

del dos mil dieciséis fue un apoyo crítico este grupo parlamentario presentó setenta y siete enmiendas a esa ley y este grupo parlamentario fue el único que solicitó comparecencias de representantes de la sociedad del gobierno de institucionales comparecencias que se sustanciaban en treinta y seis solicitudes

una serie de ellas tan solo se pudieron sustanciar por tanto el partido socialista trabajó mucho esta ley y se la trabajo mucho pero

ya de hecho con una ley una ley que ha dejado fuera como decíamos

sí que está recogido en la ley por lo tanto hagamos de la necesidad virtud y reconocer el hecho de que hoy la hostelería por primera vez tiene un nombre y se verá su nombre en una de las direcciones de la administración de euskadi

de este sector la hemos logrado era también una inquietud por parte del sector de la hostelería

hoy nos vamos un poco más contentos a casa que lo que hemos venido porque al menos hemos conseguido sacar una necesidad que era importante para ese sector ahora queda

el apoyo y el encauzamiento de las necesidades específicas que tenga el sector a través de desarrollos reglamentarios porque van a ser precisos algunos de ellos incluso quizás alguna modificación de la ley eso ya se verá pero creo que

y no es poca cosa gracias eskerrik asko corcuera

yo en la línea de lo manifestado por la señora corcuera simplemente recordar por abundar un poco

el epígrafe relacionado con toda esta cuestión así como con la cuestión del turismo y del comercio que se titula comercio turismo y hostelería por lo tanto

de la legislatura anterior con la idea clara y pactada con el sector de como he dicho en mi primera intervención

para efectivamente ayudarles que es lo importante contra una serie de planes para mejorar su competitividad muchas gracias a la señora mari carmen

benevolencia de cara a la negociación y pacto de esta iniciativa eskerrik asko eskerrik asko